al grupo de pacientes o de representantes del colectivo de pacientes de hepatitis cien

en este pleno del parlamento acerca de lo que se pretende y

empezaré diciendo que no es la primera vez que este parlamento debate acerca

o los problemas que se están derivando desde la aparición de los nuevos tratamientos porque tienen efectivamente un precio muy elevado y eso está generando determinados problemas el consejero fue interpelado hace dos viernes sobre plan tenía el departamento con el colectivo de pacientes qué recursos tenía para ofrecer al colectivo de pacientes como tratamiento así como cuántos enfermos estaban pendientes de recibir tratamiento

interpelación no se quedó conforme porque no recibió las respuestas a las preguntas que realizó es por lo que hemos hecho esta moción esta moción

una serie de decisiones que impulsen al gobierno y al consejero de salud a tomar unas decisiones con el colectivo de pacientes porque el consejero el viernes pasado nos comentó qué es lo que ha hecho la comunidad autónoma desde el catorce cuando empezaron a aparecer

qué ha hecho en el quince cuando ya los nuevos tratamientos estaban ya implantados plenamente qué ha hecho desde hace un montón de años acerca de la prevención

cuántos pacientes están pendientes de recibir tratamiento en qué fase de gravedad de su enfermedad están y

para atenderlos a todos porque la voluntad de este parlamento es que todos sean tratados y queremos saber cuánto tiempo calcula el responsable de este tratamiento de esta oferta al colectivo de pacientes cuánto tiempo calcula que necesita para acometer el tratamiento de todos porque ya sabemos que no se puede dar el tratamiento a todos a la vez

qué colectivo de pacientes está pendiente de tratamiento y cuánto tiempo hace falta para que estos reciban el tratamiento el consejero

otras comunidades autónomas u otros servicios de salud que lo hagan mejor

en euskadi no se podía hacer mejor porque faltan profesionales porque sería poco prudente utilizar estos tratamientos de una manera indiscriminada

que trate de forma indiscriminada al colectivo de pacientes sino que se les dé el tratamiento a aquellos pacientes para los cuales los médicos han prescrito

y el consejero también nos dijo que en el año dos mil quince habían gastado veintisiete millónes de euros en los tratamientos para que viéramos que efectivamente

no quieren no gastar que no es un problema económico insistió varias veces y que se habían tratado nos dijo dos tercios de los pacientes si eso es así

y si dos tercios han sido posibles los más graves

en el año dos mil quince no vemos por qué el consejero no se arriesga a decir que el tercio que falta lo podrá acometer en el año dos mil dieciséis

el caso es que nos hubo ningún compromiso

acerca de lo que este parlamento quiere saber cuántos enfermos están pendientes de tratamiento qué gravedad

según la gravedad se les clasifica en cuatro o cinco tipos de pacientes pues bien el primer grupo el de los fmenos cuatro que quiere decir que tienen ya un grado de fibrosis en el hígado muy importante o que tienen

esos teóricamente iba a estar finalizados

tratados a finales de dos mil dieciséis de modo que seguimos sin saber si nos quedan pacientes muy graves todavía pendientes de tratamiento y si el siguiente escalón de pacientes pendientes de tratamiento que serían los fmenos tres van a ser tratados en el dos mil dieciséis

da la impresión con las explicaciones que da el consejero de que esta fuera una enfermedad de nuevo diagnóstico

no tenemos médicos no tenemos hospitales no tenemos camas sí señor la hepatitis cien y otra serie de hepatitis y otra serie de problemas hepáticos existen

muchísimo tiempo y recursos sanitarios ofertados para ellos a través de médicos especialistas en hepatología

camas de digestivo específicas para hepatología las hay

pruebas de laboratorio y pruebas específicas las hay y se hacen desde hace un montón de años la única novedad es la última prueba que se incorporó ya

determinar el grado de fibrosis que tiene el hígado a través de un aparato que se denomina fibroscan tampoco nos lo ha contado el consejero toda la información que tiene este parlamento que tenemos los miembros de la comisión de salud la tenemos prácticamente porque nos la ha trasladado el colectivo de pacientes

en qué situación se encuentran cuántos de ellos porque tampoco están todos afiliados

cuántos de ellos están pendientes de tratamiento y qué grado de evolución de la enfermedad tienen toda la información que tenemos acerca del colectivo de enfermos procede de las plataformas de pacientes lo cual tenemos que reprochar a este gobierno y el consejero en particular un grado de opacidad

quiere conocer los datos usted nos dice que no es un problema económico que es un problema sanitario no sé qué problema es

tenemos poca confianza en usted poca confianza en los datos que nos da y desde luego

en el respeto a los acuerdos que hace este parlamento porque hemos hecho varios acuerdos

en el cajón de los incumplimientos la primera vez que esta parlamentaria preguntó al departamento cuantos pacientes

se le respondió que no sabíamos el departamento no sabía cuántos pacientes había

pero claro lo que todos debemos saber a continuación es que la

cualquier médico que encuentra un enfermo de hepatitis cien tiene la obligación de comunicar por tanto

conocidos están declarados en euskadi y esos datos los tiene el departamento no solo los tiene sino que además tiene obligación de enviarlos a madrid

para conocer la dimensión del problema porque este sí es un problema de salud pública una vez más

que los datos que conocemos o bien proceden del colectivo de pacientes o bien del boletín oficial porque usted no nos los ha querido dar no sabemos

lo hemos tenido que localizar en el boletín oficial aunque ahí es una adjudicación abierta que no significa que vaya a gastar está previsto quiero decir también que una vez más

llegamos porque el parlamento se empeña exactamente igual que ha ocurrido en otras cosas que usted se acordará señor consejero una de las primeras intervenciones esta no va a ser la legislatura del ladrillo como si

el ladrillo significara burbuja inmobiliaria usted quiso hacer una equiparación

construir casas para hacer negocio a construir un hospital o a mejorar un quirófano como si fuera algo semejante eso es una manipulación que no se puede aceptar y desde luego no se la aceptamos en su momento lo mismo quiero decirle

no haremos esto no haremos lo otro y luego la insistencia del parlamento le ha obligado a usted a recapacitar porque efectivamente era necesario

que el parlamento le impulse a recapacitar le impulse a traer

entre eh bildu y el partido socialista y que creemos que otros grupos también lo van a apoyar que nos traiga en dos meses lo que le hemos preguntado veinticinco mil veces oiga comprométase cumpla con el parlamento

díganos qué colectivo de pacientes tenemos pendientes de tratamiento y cuánto le va a costar tratarlos

está abierto a mejorarle el presupuesto

capítulo de farmacología en el caso de que necesite incrementar ese capítulo nada más y muchas gracias eskerrik asko

otra vez hablando de la hepatitis cien en esta cámara en el parlamento vasco y otra vez

deberes al gobierno vasco en concreto al departamento de salud en relación a esta cuestión sin duda la aparición de nuevos fármacos antivirales han supuesto un claro avance en el tratamiento de la hepatitis cien para evitar que la enfermedad

son caros pero a la vez está evidenciado y constatado que evitan el progreso de la enfermedad los síntomas que se pueda llegar al transplante e incluso como

hospitalarios en enero del dos mil quince

se creó un comité de expertos presidido por el profesor rodés y a dicho comité de expertos se incorporó un profesional de osakidetza

este comité de expertos se aprobó la estrategia para el abordaje de la hepatitis cien en el sistema nacional de salud

un hito y un reto muy importante para los diferentes sistemas de salud de las diferentes comunidades autónomas aquí

desde el partido popular y hoy también lo queremos denunciar y criticar

en relación a la falta de información que se tenía que haber dado en relación a los enfermos que ya han sido atendidos a los enfermos pendientes de atención

a los enfermos y también el tiempo necesario para dar la atención a todos los enfermos

muy gráficamente por la señora roncal están clasificados en distintas fases según el grado de gravedad a nuestro juicio y también lo hemos plasmado en los diferentes debates que hemos tenido sobre esta cuestión ha habido una dejación en la responsabilidad de este gobierno

incluso en sucesivas comparecencias y a raíz de diversos testimonios de afectados

que obviamente pues tienen la credibilidad propia de quienes están sufriendo

el perjuicio de cualquier demora en dar los tratamientos incluso teníamos noticias de que enfermos clasificados

a los que se les incluso prescribía el tratamiento no se les autorizaba

reivindicaciones presiones se fueron atendiendo algunos casos por eso también desde este grupo hemos puesto de manifiesto y hemos querido también criticar

en dar los tratamientos que como hemos visto en algunos casos ha sido evidente y notoria lejos de lo que tiene que ser criterios objetivos que deben de primar en dar este tipo de tratamientos también nosotros hemos denunciado la discriminación de los afectados de hepatitis cien en esta comunidad autónoma respecto a otras

de que pacientes de otras comunidades autónomas estaban siendo atendidos y no estaban siendo atendidos los pacientes en euskadi por lo tanto consideramos que ha habido un claro perjuicio

en euskadi sobre esto también hicimos una pregunta al consejero en un pleno de control y obviamente el consejero negó la mayor pero quiero decir que la realidad es la que es y los hechos

hemos tenido que traer aquí el debate de la hepatitis cien y nuevamente va a haber un pronunciamiento instando al gobierno vasco

los deberes en definitiva nosotros consideramos desde el grupo popular que hay una clara falta de voluntad política por parte del ejecutivo en la atención a estos enfermos

falta de voluntad política porque el propio consejero hace dos semanas en la respuesta a la

sin tratar por un problema económico también en la respuesta que nos dio a la pregunta que formulamos en un pleno de control a este grupo nos decía el señor consejero el señor darpón que no es un problema económico porque la partida es ampliable

al gobierno vasco al señor consejero si no es un problema económico si la partida es ampliable si nadie que precise el tratamiento se va a quedar si tratamiento señor consejero está el problema porque desde luego nosotros desde el grupo popular no lo entendemos sí sabemos como usted nos ha señalado aquí también en sus numerosas explicaciones en las que ha sido instado por parte de esta cámara a venir al parlamento

escalonada y que en ese sentido los pacientes eran tratados o son tratados de forma

popular que la priorización no puede la priorización en los distintos grupos y de los pacientes no puede servir de excusa

que lo precisan y todavía más grave nos parece el caso de que incluso en algunos casos se llegó a prescribir el tratamiento y la prescripción de esos tratamientos

autorización por eso desde el grupo popular presentamos una enmienda en la línea de las enmiendas que hemos presentado de los textos que hemos presentado cuando se ha debatido también esta iniciativa y en la línea de lo que reivindicamos la pregunta que formulamos instando al gobierno vasco a que garantice

de acuerdo a los criterios clínicos fijados en el plan estratégico para el abordaje de la hepatitis cien en el sistema nacional de salud aprobados por todas las comunidades autónomas la comunidad autónoma del país vasco y por otra parte en un segundo punto instamos al gobierno vasco a presentar un informe en el plazo de dos meses con el cronograma presupuesto destinado a tratar a todos los enfermos durante el año dos mil dieciséis

y la fase en la que se encuentran estas cuestiones en su

recogidas en la enmienda de transacción firmada y por lo tanto como hemos mantenido una posición de coherencia siempre

aprobaremos esta enmienda de transacción que se nos ha presentado hoy y esperemos de una vez por todas que esta sea la última vez que tengamos que traer este debate a esta cámara
dándole un nuevo tirón de orejas a este ejecutivo por un nuevo incumplimiento en los compromisos adquiridos eskerrik asko garrido andrea

zuzentzera goazena estamos hablando de una enfermedad una infección que se cronifica en un setenta por ciento de los datos

una enfermedad que tenemos oportunidad de erradicar en eso coincidimos con el gobierno recordemos que las líneas estratégicas de actuación

son las siguientes determinar la magnitud de la infección

definir un plan de actuación terapéutico y clínico asistencial

con la población en general y con las personas afectadas guzti hau ez da eh bilduren burutazioa darpón sailburuaren aginduaren arabera

honen betetze maila otra cuestión la más importante y la que más conflicto genera es el acceso de los pacientes a los antivirales de última generación

la mayoría con un grado de fibrosis muy avanzado es decir un f cuatro nosotras

nosotras la echamos en falta no sabemos si están hablando de equidad entre todas las personas

o de equidad entre los pacientes que padecen esta enfermedad más de una vez

es justo que pacientes que no están en esa fase tengan que empeorar lo suficiente para recibir este tratamiento horregatik jaurlaritzari eskatzen diogu

le pedimos al gobierno que traiga a este parlamento y en el plazo de tres meses un cronograma específico para atender a todas las personas

el grado de progresión de su enfermedad porque a día de hoy desconocemos en qué estado se incorporan al tratamiento adierazi dugun bezala

inork ez du ukatu ukatu ez aldiz praktika hori debekatu bai por tanto ya no es un problema que los especialistas prescriban estos tratamientos porque directamente no lo pueden hacer verdad tampoco sabemos cuál es el protocolo que se aplica en el caso de que el tratamiento fracase sabemos que esta situación solo se da en un diez por ciento de los casos

cuáles son las medidas que se toman en estos casos desconocemos con exactitud el tratamiento que reciben el personal sanitario que también está afectado

y mientras tanto el servicio de atención al paciente sigue respondiendo a las personas que presentan una reclamación con una carta tipo un modelo que en este caso

a todos los pacientes por igual independientemente de su situación del grado de progresión de su enfermedad o del tratamiento que estén recibiendo una carta absolutamente impersonal que en más de una ocasión también hemos denunciado amaitzeko

dator gaur berriro entzun dugun diskurtsoarekin señora roncal lo reconozco veo la realidad a través de un cristal mi cristal y cuando escucho al sailburu darpón responder a todas sus preguntas reconozco que coincido con él en su forma de ver la realidad y de actuar para mejorarla lo reconozco comparto sustrato ideológico

comparto metodología de trabajo en equipo y criterios en la gestión de recursos priorizando con criterios clínicos y de equidad

cuestión que me consta que usted también valora altamente reconozco todo ello pero hoy he querido hacer un ejercicio que me cuesta y también lo reconozco en quitarme ese cristal mi cristal y acercarme al debate que usted nos plantea sin él

sobre la falta de información del gobierno hacia el parlamento falta de datos a su juicio en lo referido a lo ya realizado y en lo referido a lo previsto por realizar

y al acercarnos a un primer análisis nos encontramos con dos documentos iniciales en este debate la justificación de su interpelación de veintidós de enero y la justificación de su moción de ocho de febrero tan solo diecisiete días separan estas dos justificaciones y simplemente leyéndolas

reconocimiento de existencia de información en la primera de ellas y constatación de falta de información en la segunda señora roncal y con carácter previo lo primero que tiene que hacer es coordinarse

desde la puesta en marcha de la estrategia para la atención de la hepatitis cien en euskadi en febrero

que ya desde enero del dos mil catorce estaba desarrollando el grupo de trabajo para el tratamiento de la enfermedad entiendo que hay tres momentos a destacar

parlamentario claves desde el punto de vista parlamentario en el ámbito sanitario muchos más hitos

moción de eh bildu en segundo lugar la comparecencia del gobierno del siete de octubre

y en tercer lugar la interpelación del pasado cinco de febrero su interpelación señora roncal el texto transado cuatro puntos

usted sabe que hicimos un gran esfuerzo por acercar posturas y trabajamos desde la creencia de que era sustancialmente mejorable

quisimos sumar pero la habitual cortesía de la señora blanco no nos lo permitió comparecencia del gobierno fundamental dando respuesta a los planteamientos básicos que recogía el texto transado

a lo que significa la estrategia de atención desde los principios en los que se basa a los datos de resultados obtenidos pasando por sus planteamientos conceptuales

escenario derivado del desarrollo científico que nos encontremos ante escenarios nuevos es algo que en el mundo de la salud ya nos ha pasado en más ocasiones

fármacos que tienen valor añadido y los incorporamos de acuerdo con la ciencia y la legalidad

sabemos que es fundamental diseñar bien para construir bien y para conseguir buenos resultados y también sabemos que es fundamental alejarnos de la improvisación una estrategia con cuatro líneas de actuación nos las ha recordado la señora blanco y no voy a hacer mayor incidencia

la primera línea el conocimiento la magnitud la segunda las medidas preventivas ese intento por controlar la frecuencia de entrada la tercera línea el plan de actuación que se nos trasladó detalladamente

además se nos trasladaron todos los datos a octubre del dos mil quince todos en unas transparencias muy visuales donde se desarrollaban multitud

cronogramas calendarios de respuesta inmediata la entrada de medicación dificultades y complejidades más concretas

un dato a modo de resumen sobre la utilización de nuevas terapias de nuevos antivirales a octubre de dos mil quince mil cuatrocientos dos personas tratadas

sesenta y siete personas afectadas un cincuenta y nueve coma dos por ciento

el tercer momento las respuestas del sailburu a su interpelación critica usted señora roncal en su justificación de esta moción al sailburu dice

efectivamente mostró solidaridad y habló de principios pero es objetivo

y en este momento no tengo colocado ningún cristal que no solo hizo eso estaría quizás despistada en ese momento y luego es cuando tiene que acudir al boletín oficial y estas cosas que nos ha contado pero no solo hizo eso

nos recordó las líneas básicas de la estrategia y además de eso fundamentalmente nos aportó datos si yo tuviese que poner una pega a su respuesta a la respuesta del sailburu le diría que es una respuesta demasiado cargada de datos

encontramos todas las respuestas a sus dieciséis preguntas las ocho que realizó en el primer turno y las ocho que realizó en el segundo turno léala léala actualiza los datos que se nos dieron a octubre de dos mil quince los actualiza a diciembre de dos mil quince

mil cuatrocientos dos a modo de resumen octubre del dos mil quince mil cuatrocientos dos que hemos comentado sobre dos mil trescientos sesenta y siete

mil quinientos treinta y tres sobre dos mil trescientos sesenta y siete

octubre a un sesenta y cuatro coma ocho casi un sesenta y cinco enero del dos mil dieciséis mil seiscientos sesenta y seis

un setenta coma cuatro por ciento sesenta sesenta y cinco setenta cada vez más cerca del objetivo

ustedes tampoco lo ven sesenta sesenta y cinco setenta mes a mes

y siguiendo ese dicho universal de que no hay mayor ciego que el que no quiere ver

que usted no quiere ver ustedes señora roncal son conscientes que están transmitiendo una falsa imagen ustedes saben que no hay ni una sola persona en euskadi que se encuentre afectada por esta enfermedad ni por ninguna otra a la que se le niegue el tratamiento disponible más adecuado allá ustedes con esta responsabilidad este es un desafío complejo no es una cuestión meramente económica es un reto sanitario

experiencias escenarios cambiantes profesionales consultas controles

un desafío complejo y es un reto un reto al que nos enfrentamos garantizando una realidad todos los afectados están perfectamente atendidos

un reto que supone una gran oportunidad hacer desaparecer una enfermedad y es un reto en el que todas las personas de nuestra comunidad vamos ganando sesenta
setenta unos buenos datos una buena noticia eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos

socialista que ante la falta de información suministrada por el gobierno al parlamento vasco nos encontramos con dificultades para saber si se ha finalizado el tratamiento

e incluso el número total de afectados por esta enfermedad a fecha de enero de dos mil dieciséis creo que lo que pone de manifiesto esta justificación es

del gobierno vasco creo que es una queja que compartimos todos los grupos parlamentarios y esto creo que en parte es consecuencia de la cabezonería del señor

y fuera capaz de explicar mejor las cosas bien que hace creo que valoraríamos efectivamente ese buen trabajo cuando se ha producido en el caso de que se haya producido en la interpelación realizada al consejero de salud

a quienes sus médicos les hayan prescrito dichos tratamientos cuál era su estrategia

así como el número de pacientes pendientes de tratamiento y el dinero destinado en dos mil quince y el previsto para dos mil dieciséis ante dicho requerimiento compartimos con la señora roncal que el consejero se limitó básicamente a mostrar su solidaridad con los enfermos así como a decir

y la calidad a pesar de que existe un tercio de pacientes aún por tratar la señora roncal en esa interpelación resume la situación que los enfermos se califican de fmenos uno a fmenos cuatro en función de su grado de fibrosis que los tratamientos están priorizando

que los nuevos fármacos son muy caros pero que los tratamientos convencionales también lo son la señora roncal recuerda que el parlamento ya se pronunció a favor de dar tratamiento a todos los enfermos de hepatitis cien independientemente de su grado de afección no solo

la señora roncal pregunta al consejero si han finalizado los tratamientos

para enero de dos mil dieciséis cuánto se destinó en dos mil quince y cuánto se va a gastar en dos mil dieciséis cuál es la estrategia para dos mil dieciséis

a todos atendiendo únicamente a criterios médicos y de equidad el señor darpón informa de los comités que se crearon y de la estrategia aprobada en dos mil quince y le devuelve la pregunta a la señora roncal preguntándole

en algún lugar del mundo o si alguna comunidad autónoma está tratando a todos los pacientes

y porque sería poco prudente por la falta de experiencia y por los continuos cambios en los tratamientos

y que tal actuación supuso un costo de veintisiete millónes de euros

afirma que en dos mil quince se ha tratado a las dos terceras partes de los pacientes censados y conocidos en los hospitales en el momento de definir

confundiendo este parlamento con el congreso de los diputados dice que en españa se puso como horizonte para esos tratamientos tres años y aquí se ha conseguido hacerlo en un año pero

pensamos que siempre hay margen de mejora y esto es lo que nosotros pretendemos también con el apoyo a esa transaccional que han firmado dos grupos parlamentarios la señora roncal le pregunta si ese tercio restante se va a tratar este año y le reitera las mismas preguntas de la primera intervención

y de los que tienen bajos índices de fibrosis de los que han respondido mal al tratamiento y de los nuevos pacientes que van apareciendo a partir de ahí la moción presentada por el grupo socialista que ha sido

finalmente presentar a votación esa transaccional que se ha firmado en su momento nosotros apoyamos que el tratamiento fuera universal para todos los afectados

en que todos los enfermos tienen derecho al tratamiento ya está tratada la práctica totalidad de los enfermos más graves y algunos de los otros estadios con menos fibrosis

a todos los demás pero efectivamente como insistimos todos los grupos falta transparencia

claro por parte del departamento de salud y ya digo que creo que esto se produce como consecuencia de la cabezonería del consejero si dejara al margen esa cabezonería seguramente

sería mejor visto por el conjunto de la cámara y por los propios enfermos y por parte de toda la ciudadanía en fin

claridad información y actúe con la máxima transparencia pero en todo caso se debate y se vota una transaccional y yo

creo que todos ellos son reivindicaciones justas se insta al gobierno a que garantice el tratamiento con los nuevos antivirales a todas

y sin reparar en el coste económico que ello suponga se pide al gobierno la elaboración de un cronograma específico para atender a todos los enfermos

se pide al gobierno que presente un informe detallado del presupuesto destinado a la cobertura

y finalmente como no podía ser de otra manera nos solidarizamos con los enfermos y pedimos que los enfermos y todos nosotros en definitiva podamos a la máxima información posible en definitiva creo que son reivindicaciones justas y por lo tanto pienso que esta transaccional podía ser
por todos los grupos de la cámara también por el grupo nacionalistas vascos nosotros en todo caso votaremos a favor gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias presidenta el parlamento es un recinto protegido aquí cada uno viene y dice lo que le parece pero hoy

tenemos testigos y es un colectivo de pacientes

ustedes creen que si no tuvieran necesidad de tratamiento

que demanda tratamiento seamos serios no

hay un colectivo de pacientes que demanda tratamiento porque no lo recibe porque no lo recibe qué les parecería a ustedes que viniera no voy a poner el ejemplo del cáncer no que ya lo he puesto en alguna otra ocasión un diabético diagnosticado de diabetes y le dijéramos

haga dieta y cuando esté ciego vuelva que ya le ayudaremos entonces o cuando necesite trasplante renal

pues eso es lo que se ha hecho lo que pasa es que no estamos siendo tan dramáticos pero ya ha habido fallecimientos

no ha recibido el tratamiento y para cuando le han llamado había fallecido es verdad que son los menos

están siendo tratados pero es que en la estrategia que se aprobó en madrid con la participación de todas las comunidades autónomas ya se decía empezar por los más graves pero continuar con los otros ya está bien de tomadura de pelo oiga equidad

y los otros cuando estén graves que vuelvan no no equidad es tratar a todos según su necesidad según su necesidad

y los que tienen otras enfermedades añadidas a la vez empezamos con esos pero no vamos a exigir

evolucionen a más gravedad para recibir el tratamiento lo mismo

que enfermos están aunque no tengan tan alterado el hígado enfermos están y tienen un montón de virus

de enfermedad eso no se está haciendo tanto como mirar solo la afectación del hígado y ya lo dijo también el presidente del comité ese que aprobó la estrategia de tratamientos

que no tienen afectación del hígado están enfermos y también necesitan tratamientos es decir necesitan tratamiento todo el colectivo de paciente

todos y algo está fallando en la sanidad vasca

mire usted luego vamos por ahí presumiendo de que somos los más ricos de los que más gastamos por persona

en tratamientos al colectivo de hepatitis cien o a cuántos ha tratado

que lo sepa somos los que teóricamente gastamos más por paciente perdón por habitante

desde luego al colectivo de pacientes de hepatitis cien no le está llegando con la debida necesidad

y más ajustarse el cinturón con otras cosas y dar tratamiento a todo el colectivo y decirnos cuánto tiempo va a tardar este tratamiento como no es un problema económico y le creemos pues espero que usted cumpla

todos en el dos mil dieciséis porque un tercio son quinientos y pico

haga las cuentas le quedan poquísimos porque me imagino que los nuevos diagnósticos de hepatitis no conocidas hasta ahora serán con goteo

que estaban enfermos y no lo sabían serán unos pocos así que volvemos a decir al colectivo de

que estamos con ellos creemos que todo el colectivo debe de recibir el tratamiento

cuándo van a recibir el tratamiento cuánto tienen que esperar cuándo van a recibir el tratamiento y
cuándo se les va resolver su problema nada más y gracias eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea bueno yo creo que el tema está claro los hechos están ahí
la reivindicación de los enfermos está plasmada

y también está claro la actitud de este gobierno en relación a esta cuestión

cuando el propio consejero pues ha señalado en reiteradas ocasiones que no era un problema económico cuando el propio consejero

fue un poco de farol por decirlo de alguna forma cuando el gobierno de españa

arbitraron medidas específicas para ayudar a financiar a las comunidades autónomas los nuevos tratamientos para la adquisición de los nuevos fármacos antivirales y aquí se dijo que no que no hacía falta dinero porque aquí parece que

esa posibilidad de financiación de los nuevos fármacos y nos encontramos

eso sí el consejero en reiteradas ocasiones y cada vez que se habla de este tema nos señala que no es un problema económico por lo tanto concluimos que es un problema

a esta cuestión lo cual nos parece más grave cuando encima el consejero parece ser que tiene el dinero disponible y parece ser además cuando el consejero mismo ha dicho aquí que esa partida es ampliable por lo tanto cuando estamos ante una partida ampliable

para atender a las demandas existentes y a las necesidades existentes que parece ser y a tenor de los datos que están ahí y de los propios datos que dio el consejero todavía

que están sin atender y los hechos son incontestables también en el sentido de como se ha denunciado por parte de la plataforma y enfermos que han venido a este

no estarán por amor al arte organizados en una plataforma reivindicando lo que están reivindicando

los deberes decía que es evidente también que aquí en esta comunidad autónoma

pioneros en muchos tratamientos en la prestación de muchos servicios en esta materia concreta nos hemos quedado los últimos de la fila y los últimos de la cola clara de voluntad de este gobierno y de este departamento iba a dar las cifras pero bueno ya las ha dicho la señora roncal y además bueno pues ha citado una comunidad autónoma que creo que está siendo

a estos pacientes con esta nueva iniciativa señor consejero y no creo que el tema sea

a los enfermos en este hemiciclo oyendo estas intervenciones

el gobierno vasco haga los deberes y haga lo que tiene que hacer que es en este caso atender a todos los enfermos afectados

en esos criterios de equidad de solidaridad como se está haciendo en el resto de españa eskerrik asko garrido andrea

aldeko bozka eta gauza pare bat esateko aiartza jaunari los pacientes seguramente que agradecen su solidaridad pero seguramente no es eso lo que quieren lo que quieren son soluciones

para escuchar cómo usted se solidariza con ellos seguramente que esperan algo más de este parlamento usted

que mira que le recomiendo sinceramente que les pase un pañito porque alguna que otra mancha tienen dice que se pone de lado del gobierno no hace falta que lo diga viendo su enmienda

de intentar comprender al resto de los grupos de esta cámara pero como le digo viendo su enmienda nos parece difícil de entender

que se sigan desarrollando en detalle las cuatro líneas de actuación del gobierno esas que tantos buenos resultados se están obteniendo con ellas

en orden a la erradicación de esta enfermedad viendo esta enmienda no sé cómo quiere usted cómo espera usted que intentemos llegar a un acuerdo porque en base a esto seguramente hoy no estaríamos debatiendo aquí si lo que queremos es mantener que continúe todo como hasta hoy pues no estaríamos perdiendo el tiempo pero es otra cosa

de grupos a usted de verdad que no le da qué pensar no le da qué pensar

como eh bildu upyd partido popular

para aprobar lo mismo no le da a usted qué pensar toda la oposición y usted y el gobierno estaría bien que dejase

actuar como portavoz del gobierno en este caso y solidarizarse sí pero con hechos con los pacientes

en la segunda intervención pero como no puedo volver a salir algo más le voy a decir

sí de sainetes y no sé qué más bien

nosotras lo que demostramos con nuestros hechos y con nuestros discursos es sensibilidad y empatía para con los pacientes cosa que en usted

con lo que han dicho otras portavoces por lo tanto no nos vamos a repetir simplemente decir que si en esta ocasión

por puntos voy a hacer ese ejercicio y voy a ser igual de buena que el señor iturrate

eskerrik asko efectivamente señora blanco me da que pensar

creo que es evidente lo que pienso una estrategia completa es una estrategia completa frente a pequeños detalles o pequeñas

que alguno en sus ocurrencias lanza no son pequeñas acciones es una estrategia completa tratar una cuestión desde una estrategia completa

y los resultados están y además veremos muchísimos mejores resultados pero ya son muy buenos gracias al señor maneiro

aunque no coincido con usted con el inicio del mismo usted

hemos podido constatar que efectivamente el consejero iba contestando a todas las preguntas que le hacía la señora roncal una por una esas ocho en el primer turno y

las ocho en el segundo turno un estupendo resumen muchísimas gracias margen de mejora

y en eso estamos respecto a la sanidad comparada que nos hablaba también la señora roncal también la señora garrido

centrarnos o que nos centremos en lo nuestro pero nos hablaba de ocho mil tratados en madrid y usted lo ha traído aquí cuántos faltan por tratar en madrid

no nos cuente que es madrid que somos nosotros nosotros estamos centrados en los nuestros y nosotros sabemos dónde estamos sesenta

de la erradicación cuántos faltan cuántos faltan en madrid más cerca que ayer y su teatralización y siguiendo las palabras

esa forma de teatralizar delante de personas que sufren con ese primer capítulo que no se ha dado aquí que se dio en otro momento con esa pequeña enmienda al presupuesto sí parte del teatro parte del teatro solidaridad sí solidaridad es esencial es esencial y seguimos en la solidaridad pero no solo en la solidaridad seguimos en la solidaridad y en la acción y ustedes lo saben y ahí están los datos cuando estamos enfermos es duro esperar es duro esperar al avance de los tratamientos

de la investigación pero cuando estamos enfermos también sabemos valorar los avances sesenta sesenta y cinco setenta también los enfermos sabemos saben valorar los avances solicitaremos

roncal y a la señora blanco la votación por puntos eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

como hace quince días cuando presentaba una interpelación sobre este asunto al señor lehendakari seguimos inmersos en el periodo de conversaciones para la formación

y en ese contexto de conversaciones abiertas por el candidato socialista para recabar apoyos a su investidura

la cuestión territorial acapara cada vez mayor protagonismo sin ir más lejos la propuesta de acuerdo presentada esta semana por podemos al candidato pedro sánchez

y la petición de un estado plurinacional y hace quince días como decía interpelaba yo al lehendakari con la intención de que expusiera

de la consecución de ese nuevo estatus político era una cuestión preferente en los asuntos a plantear en el curso de las negociaciones para formar gobierno en españa si el derecho a decidir el derecho de autodeterminación la secesión su disposición a promover una consulta legal y vinculante va a estar sobre la mesa en las conversaciones con el señor sánchez pudiera parecer que sí

relativo al reconocimiento de la nación vasca en el derecho a decidir y en reclamar un nuevo estatus para euskadi sino

por la consecución de una nación vasca plasmada por ley parece pues ser una prioridad para negociar el reconocimiento de un estado plurinacional en la que no haya

y como decía antes también el señor iglesias ponía en el centro de las negociaciones esa misma exigencia una reformulación del estado para hacer de españa un país

que para el reconocimiento de estas reivindicaciones plurinacionales sería necesaria una profunda transformación de la constitución no se puede ni se debe engañar diciendo

no es cierto el modelo territorial y el marco de convivencia recogido en nuestra constitución y refrendado por los españoles es incompatible con la existencia en españa de distintas naciones esto hay que dejarlo claro desde el principio y es que como decía el señor iglesias añadía esta misma semana

conviene por tanto poner de manifiesto que determinadas cuestiones y la cuestión territorial y el marco de convivencia es sin duda una de ellas no puede ser

o más formaciones políticas y no puede serlo porque no les corresponde porque corresponde al conjunto de la sociedad española cualquier decisión sobre las mismas y ese

entendemos desde el grupo popular que el respeto a la soberanía nacional que reside en el conjunto de los españoles es incompatible

en la que una parte de los españoles decidan por todos los demás la cuestión es saber si todos los demás grupos

será bueno dejar algunas cosas claras por la poca concreción del candidato socialista en esta materia cuando no dudosa y su ambición política personal de ser investido presidente del gobierno

para los intereses del conjunto de los españoles falta de concreción como digo y necesidad de apoyos políticos

está siendo aprovechado por otras formaciones políticas en beneficio de sus propios intereses partidistas y dispuestos a sacar provecho

y la necesidad política unidas a la ambición personal del candidato socialista respetamos como es lógico y como no podía ser de otra forma el derecho

en aras a un acuerdo político entre dos o más formaciones pero de la misma manera que respetamos esto nos parece también importante poner de manifiesto por todos la voluntad de preservar el marco de convivencia y respeto mutuo amparado en la constitución del setenta y ocho porque si la suma

y el interés político de quienes pueden apoyarle da como resultado el cuestionamiento de nuestro marco de convivencia democráticamente elegido y refrendado por todos los españoles

da esa suma entonces apaga y vámonos cómo va a ser capaz el señor sánchez y el partido socialista

apoyo para formar un gobierno de estabilidad si esos respaldos de cuestionar nuestro principal marco de convivencia la constitución no debería de ser capaz porque esa decisión no le corresponde ni al partido socialista ni al partido popular ni a ningún otro y tampoco le corresponde al partido nacionalista vasco por mucho interés que este tenga en poner patas arriba el sistema institucional consagrado en mil novecientos setenta y ocho cualquier decisión que se tome en esa dirección

a los españoles a todos los españoles y desde luego tiene que ser resultado al menos

del que fueron capaces nuestros predecesores en la transición democrática y no es suficiente

en gestos teatrales se echen las manos a la cabeza y pongan el grito en el cielo cuando pablo iglesias presenta sus condiciones para prestarle apoyo y entre ellas sitúa

y como una condición además irrenunciable no es suficiente

que el señor iglesias no sabe dónde está o no se entera de nada porque ustedes señores socialistas

están siguiendo la estela del señor sánchez en su desesperada carrera hacia la moncloa ustedes no están siendo claros

están en un alarde de manga ancha que no tiene ningún sentido

como los de podemos que no es nuevo por cierto al menos deben de reconocer que detrás de esa

y reconocerán también que esa estrategia de sonrisa fácil con algunos le está fracasando porque el señor iglesias le ha vuelto a responder de la misma manera

porque los diputados de democracia y libertad le han dicho que solo se abstendrán si hay referéndum catalán porque los nacionalistas vascos les están planteando también sus exigencias

porque tampoco están siendo precisos y claros en sus conversaciones con el partido nacionalista vasco y por eso hoy vuelve a estar en debate la transferencia de la seguridad social a euskadi ni menos que la viabilidad de las pensiones de los vascos un sistema fundamental es la solidaridad consagrada también en la constitución el nacionalismo erre que erre

a sabiendas de que somos deficitarios a sabiendas de que las pensiones de los vascos no serían viables porque en euskadi se ingresa menos de lo que se gasta

señores del partido nacionalista vasco y ustedes lo saben perfectamente

que no es cuestión de eficacia ni de mejora en la gestión que no es así ustedes lo saben perfectamente pero es que a ustedes eso no les interesa es que tampoco les interesa la gestión

un sistema propio de seguridad social porque además la transferencia de la gestión de la seguridad social es una de las metas volantes

y por eso también está sobre la mesa de negociación con el señor sánchez porque el partido nacionalista vasco está también dispuesto a sacar tajada de la debilidad y de la necesidad

porque el nuevo estatus político que el nacionalismo pretende para euskadi se basa precisamente en eso en tener el control institucional de todo

también de aquello que la constitución del setenta y ocho confirió a la administración del estado por mucho que en este caso esté en cuestión la pensión de los vascos esa pensión que con tantos esfuerzos y con tantos sacrificios se han ido ganando con su trabajo y con seguridad que en ese paquete además de la seguridad social estará también el derecho a decidir

la relación bilateral con el estado es decir otra forma de reclamar

el derecho de autodeterminación y la independencia creemos que es importante salvaguardar de la negociación política cuestiones que nos afectan a todos a todos los españoles y sobre los que la capacidad de decisión a quien corresponde es a todos los españoles creemos

el compromiso con la legalidad constitucional con el estado de derecho con la democracia y con la convivencia entre españoles ese es el objeto de esta iniciativa

cuál es el marco de la negociación establecer si todos tenemos claro el tablero de juego en el que nos movemos porque en esta partida jugada por el señor sánchez él podrá extender sobre el tablero de juego sus tácticas

pero sobre lo que ni el señor sánchez ni otras fuerzas políticas pueden acordar es sobre el propio tablero de juego porque este fue decidido entre todos los españoles y consagrado

si se le quiere dar otra forma entonces habrá que decidirlo de nuevo entre todos los españoles

al menos con el mismo grado de consenso que en el año setenta y ocho

solo les interesa llegar al acuerdo que consiste en ser investido presidente en marzo como si no hubiera un mañana después de ese día eso le importa poco

presidente cueste lo que cueste a otros

ese acuerdo para poder utilizar la ansiedad del señor sánchez en beneficio propio y conseguir sin modificar la constitución saltándose la constitución por la vía de los hechos un reconocimiento como nación y a nosotros nos preocupa que dentro del contenido de ese acuerdo

porque los partidos no pueden disponer de ellas porque pertenecen al conjunto de los ciudadanos el reconocimiento de españa como nación que la soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles

la igualdad de todos los españoles la solidaridad entre ellos el cumplimiento de la ley son pilares básicos que no pueden ser cuestionados

al albur de negociaciones políticas por muchas urgencias o muchas ansiedades que se tengan creemos por tanto que los grupos en esta cámara deben posicionarse claramente

cualquier cuestión aunque sea la constitución española

y la consideración de españa como nación la solidaridad y la igualdad entre los españoles también pueden ser objeto de concesiones y negociaciones políticas para llegar a ser investido presidente o si sobre todas esas cuestiones son un previo

moción planteada por el grupo popular está bien pero es insuficiente el partido popular lo que viene a plantear es

los límites legales nuestro marco de convivencia y la preeminencia de la constitución española y nos avisa de los males que vendrían en el caso de que

ante las presiones de los nacionalistas o de los soberanistas o de los independentistas

defensiva es una moción insuficiente es una moción en parte acomplejada es una moción

de un partido político que lo que viene a decir es que hay que dejar todo como está y que

no tenemos alternativa política a los nacionalistas que nos acechan y por eso considero que esta moción

en cada uno de sus puntos es insuficiente porque efectivamente todo lo que se recoge ahí es cierto hay que respetar la constitución española el futuro del país lo decidimos entre todos y evidentemente la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles siendo esto así hay que decir o hay que poder decir algo más hay que presentar una alternativa atractiva que pueda ser apoyada por una mayoría

sino también en euskadi sobran complejos sobran a otros partidos políticos y lo que hay que poner sobre la mesa es que es lo que cada uno de nosotros defendemos para beneficio del conjunto de la sociedad por lo tanto el partido popular señala lo que no debe permitirse está bien como digo pero es insuficiente pero no basta con criticar al resto

cada uno expliquemos qué queremos hacer si es que queremos hacer algo no basta por lo tanto con criticar a los nacionalistas hay que plantear una alternativa

hay que ganar la batalla política a los nacionalistas hay que convencer a los ciudadanos por lo tanto

las ideas de muchísimos ciudadanos son mejores que las ideas nacionalistas que la aplicación de nuestras ideas y nuestras propuestas vendrían bien inmensa parte de la sociedad vasca y española y ciertamente en la política vasca especialmente ha habido demasiados complejos en los últimos tiempos y ciertamente el partido nacionalista vasco pues se va consolidando en sus posición políticas por lo tanto no basta con criticar al resto

una alternativa sin complejos y defenderla allí donde estemos en todas las instituciones y también en la calle yo observo que en españa hay básicamente cuatro

los inmovilistas quieren dejar todo como está para mantener sus propios privilegios porque les beneficia a ellos consideran que

hay que cambiar nada además están los rupturistas es decir quienes pretenden saltarse la legalidad vigente y avanzar hacia la ruptura del estado y hacia la independencia están los que plantean reformas pero reformas que

porque lo que básicamente ofrecen es más nacionalismo de más defensa de lo común más desigualdad en lugar de defender más igualdad y ahí efectivamente podemos colocar a determinados partidos políticos ahí también hay complejos evidentes porque lo que euskadi

no es más nacionalismo no es más desigualdad sino que es menos nacionalismo más solidaridad más igualdad y más ciudadanía compartida y finalmente como cuarta posición política están o estamos los que planteamos reformas para modernizar españa

la igualdad incluidas reformas constitucionales profundas evidentemente a través de los procedimientos legales establecidos teniendo evidentemente claro

recoge el partido popular en su moción y que upyd ha venido defendiendo durante los últimos años que la reforma de la constitución española la decidimos entre todos que la ciudadanía

que la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles y que una parte de los ciudadanos no puede decidir dejando al margen al resto de los ciudadanos españoles pero hay que cambiar el discurso hay que hacer el discurso más atractivo no hay que decir que

porque los que realmente están en contra del derecho a decidir son los nacionalistas porque lo que pretenden los nacionalistas en el fondo es que haya una parte de los ciudadanos que no puedan decidir

y esta es la cuestión porque lo que pretende el nacionalismo lo que pretende el partido nacionalista vasco lo que pretenden los nacionalistas catalanes es que determinados

puedan votar o decidir ellos solos y esa es la enorme falacia y esa es la falacia del derecho a decidir defendido y reivindicado por

todos sobre lo que a todos nos afecta yo no quiero hablar de podemos ni

ni de siglas concretas o de determinados partidos políticos o de sus diferentes estrategias para formar gobierno o no en españa yo quiero expresar lo que creemos que debe hacerse y hacerse cuanto antes y es algo que está perfectamente recogido en nuestra enmienda de totalidad

al congreso de los diputados al gobierno de españa a impulsar sin miedo

para promover un estado federal simétrico y solidario conformado por comunidades autónomas todas ellas con las mismas competencias se cierre la distribución de competencias entre el gobierno central comunidades autónomas y los entes locales

y asuma el estado una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias clave con el objetivo de modernizar el modelo de estado blindar la igualdad ciudadana como principio irrenunciable y proteger en última instancia el interés general del conjunto

que este parlamento declare que en un estado social y democrático de derecho como españa nadie está por encima de la ley y no puede permitirse trocear el cuerpo de la ciudadanía

único que puede ejercer por los cauces legalmente establecidos el derecho a decidir sobre la unidad del país y los derechos del conjunto de los ciudadanos

y la propia constitución corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles y debe llevarse a cabo a través de los procedimientos legales establecidos en esa enmienda recogemos lo que en nuestra opinión debe hacerse porque hay muchas cosas que deben hacerse y cuáles son los procedimientos

y una máxima que a veces olvidamos el problema en españa durante los últimos años no ha sido tanto la presión de los nacionalistas que también sobre todo los complejos de los que supuestamente no son nacionalistas pero se han venido comportando como si lo fueran y ese es el asunto por lo tanto tratar de conformar

que impulse las reformas que españa necesita independientemente de lo que planteen los nacionalistas aunque evidentemente compartimos con el partido popular que lo que está recogido en esa moción debe también recordarse el señor pedro sánchez está legitimado para tratar de formar gobierno de hecho yo el día veintiuno de diciembre estaba convencido

y está legitimado para ello de la misma forma que el señor rajoy estará legitimado en el momento en que pedro sánchez no lo consiga si es que finalmente no lo consigue qué es lo que nosotros les décimos a ambos dos y a algunos otros

no cedan ante los nacionalistas que defiendan el interés general que no asuman los planteamientos de quienes no creen en el estado como por cierto se ha hecho permanentemente en el pasado y que no permitan que quienes quieren aprovecharse de la debilidad del estado alcancen sus objetivos básicamente más ventajas políticas

esta es en nuestra opinión lo que debe hacerse lo fundamental de lo que debe hacerse sabemos lo que quieren los nacionalistas sabemos que pretenden romper el estado lograr más ventajas políticas más privilegios económicos

el asunto no es ese el asunto es qué hacemos los que no somos nacionalistas y cómo ponemos en marcha cuanto antes esas reformas indispensables que serían muy buenas para una mayoría social en españa el asunto no obsesionarnos por lo tanto tanto con lo que pretende el partido nacionalista vasco sino hacer lo que en nuestra opinión redundaría

gracias presidenta pues tengo que reconocer que salgo un tanto perplejo

porque o me he equivocado yo de foros señora llanos o usted no sabe dónde está

aquí no se está gestando el nuevo gobierno de españa no está pablo iglesias yo no soy pedro sánchez usted no es diputada aunque a lo mejor le gustaría serlo y por eso ha hecho esa intervención

del tancredismo político en el que se ha instalado y que se va a llevar a su partido liquidado por corrupción

que roza el ridículo político perdone que le diga que roza el ridículo político tienen que estar ustedes muy nerviosos señora llanos si el señor rajoy para disimular su inactividad y su absoluta indolencia necesita

para ver si así parece que el cadáver político del señor rajoy tiene algún que otro espasmo

tenga usted claro que no lo ha conseguido en absoluto pero bueno yo me voy a intentar centrar en esta cosa tramposa que usted nos ha traído hoy aquí y podremos decir que estamos otra vez en el día de la marmota de lo que ha sido un asunto muy recurrente en esta legislatura un debate

el pnv y su gobierno establecen en su programa de gobierno la consecución de un nuevo estatus como uno de los ejes prioritarios de su acción esta legislatura e incluso pusieron fecha para un refrendo en el año dos mil quince aunque luego han hecho todo lo posible para escamotear

de modo que a estas alturas de la película no sabemos todavía si en lo que está pensando el pnv es en una actualización del autogobierno tal y como establece el estatuto de gernika o si lo que plantea en realidad es otra cosa

suelta por ahí por su parte ustedes el partido popular

lleva todos estos años tratando de conseguir mediante iniciativas parlamentarias que los grupos nacionalistas renuncian a serlo y se conviertan a la fe de la constitución

en el pleno de control anterior y que tenía el siguiente y enrevesadísimo enunciado cuáles son los propósitos del lehendakari para que la formación del nuevo gobierno de españa pueda suponer la consecución del nuevo estatus político y la relación de bilateralidad anunciadas en el último debate de política general

por lo que el grupo popular insiste con una moción doctrinal que sabe usted que no nos va a conducir exactamente a ningún sitio porque lo que proclaman ella puede ser muy estimable y sensato para quienes creemos que la constitución es garantía de libertades y que junto con el estatuto dibujan un marco de convivencia abierto a todos

y llevamos ya mucho tiempo señora llanos ni sus señorías del pnv ni los de bildu van a cambiar de credo

que ustedes plantean les induzca a ir más allá en su posición y a suscribir declaraciones conjuntas de principios sobre cuya aplicación después discrepan por separado no obstante mi grupo respeta por supuesto su derecho a presentar las iniciativas

y sobre todo respeta lo que representa esta cámara no como usted que parece que estaba hablando en otra

hacia un terreno práctico y útil proponemos lo que ya veníamos diciendo por activa y por pasiva en la ponencia de autogobierno y fuera de ella que dado que incluyó la elaboración de un nuevo estatus como uno de sus tres ejes de actuación

que ordene las aportaciones realizadas en la ponencia de autogobierno en un texto articulado para que se pueda producir un debate ordenado y fructífero sobre una actualización del autogobierno

y bajo las garantías y los cauces legales previstos porque ya se está viendo que el método de trabajo impuesto en la ponencia por el pnv con el apoyo de bildu

y tampoco somos ingenuos ya estamos viendo hacia donde apunta los propósitos avanzados por algunas fuerzas pero nosotros estamos abordando ese debate con la voluntad de buscar acuerdos

que fue el espíritu del estatuto reforzando el consenso existente hasta ahora y con el ánimo de ofrecer un mejor autogobierno para el progreso y cohesión de la ciudadanía vasca

que anima la propuesta detallada de actualización del pacto estatutario del setenta y nueve que presentamos hace más de un mes en la ponencia y que defendimos ayer mismo de forma monográfica

que nos constituye como comunidad política y ha situado a euskadi en un estadio de progreso y cohesión social en los últimos años y eso parece que es indiscutible aunque algunos no lo reconozcan pero tampoco queremos hacer sordina de las disfunciones que se han producido en ese desarrollo estatutario

para superarlas y por eso proponemos abordar previamente una reforma de la constitución

que evite las invasiones competenciales por parte de la administración central

que se sienten singulares porque esta reforma previa daría plena seguridad jurídica a los cambios que después se pudieran hacer

pero también estamos dispuestos si así se decide a acometer ya la actualización del estatuto sin esperar a la reforma de la constitución y hemos identificado los puntos concretos

incluida la culminación de las transferencias pendientes como la de la gestión del régimen económico de la seguridad social pero queremos que su traspaso sea de acuerdo

artículos dieciocho punto dos y disposición transitoria quinta

y dentro del carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad que definen a la seguridad social

no según una interpretación forzada del pnv que traduce convenios en plural y letra pequeña por concierto económico con caja separada y cupo

un instrumento que está pensado para los impuestos a las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas algo para lo que el concierto no tiene nada que ver es esta una interpretación

y del que tenemos que dudar de que esté de verdad interesado en asumir de forma estatutaria tal como dice el estatuto la gestión del régimen económico de la seguridad social porque en su asamblea de la pamplona ha anunciado que su aspiración es otra es crear una seguridad social propia

y también nos ha dicho que esa seguridad social segregada y mixta solo la podrán pagar quienes tengan un plan de pensiones privado y por lo tanto no podrá ser

que tengan los recursos suficientes para poder pagarse esos planes complementarios de pensiones y eso no es lo que dice el estatuto ni es nuestro planteamiento

al servicio de los ciudadanos del siglo veintiuno de la ciudadanía en su conjunto

o de pertenencia en clave social y de progreso y de carácter igualitario para todos los ciudadanos no para dar satisfacción a aspiraciones nacionalistas muy legítimas

define un estatuto más social más útil y más avanzado no es desde luego un estatuto socialista pero desde luego no vamos a avalar tampoco un estatuto nacionalista los socialistas vamos a seguir defendiendo la pluralidad de la sociedad vasca y la libre identidad de las personas y estamos dispuestos a participar

en la renovación del pacto que dio lugar a la actual estatuto esa es la voluntad con la que queremos trabajar en la actualización esa pensaba yo ingenuamente que era el objeto de esta pnl pero ya he visto que no

que era demostrar aquí o tratar de paliar el nerviosismo absoluto y el pánico en el que está instalado especialmente el señor rajoy al que por cierto todo el mundo
le considera un cadáver político aunque él parece que todavía no lo sabe eskerrik asko

es incompatible claro el reconocimiento a la soberanía nacional es incompatible con cualquier tipo de referéndum o consulta ciudadana sobre lo que es y debe ser españa en la que una parte de los españoles decidan por los demás zuk oraindik ez zera jabetu guk ez daukagula katalanek ez dutela

qué nos ha traído hasta aquí y lo décimos en nuestra aportación por escrito nos ha traído hasta aquí

la actitud renuente y muchas veces frontal que han tenido los distintos gobiernos de españa para admitir esa denominada bilateralidad

en un sistema teórico de garantías que es irreal que siempre le obliga a la comunidad política vasca o a la

esto es lo que nos ha traído hasta aquí a la necesidad de tener que actualizar la voluntad política en la materia del autogobierno todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de sujeto político pueblo vasco y derecho a decidir y en su caso pactar el ejercicio pero el ejercicio que ha hecho el partido socialista

ez baldin bada si no se modifica la constitución española no va a haber avances sustanciales y si no se dice por supuesto en qué dirección se apunta de forma difusa lo del estado federado asimétrico

de las competencias indelegables por ejemplo cuando después se habla

individuales asociados a los servicios públicos no se define todo eso no se sabe exactamente qué modelo propone y hace una determinación

pero siempre bajo el cedazo de lo que como doctrina ha podido

el partido socialista propone dos modificaciones en el preámbulo una para introducir nominalmente la palabra nación

este país ha sufrido y en cuanto a definición concreta del haber competencial o del fondo de poder hace

competencialmente cuáles serían las materias afectadas o relacionadas a la comunidad de euskadi y por supuesto nuevamente con la necesidad de

se sabe seguro que sin el partido popular no se obtiene la mayoría cualificada luego no va a haber modificación de la constitución española

al gobierno vasco para que podamos centrar el debate eso es un ejercicio de escapismo de no pronunciamiento y claro usted después cita

la referencia entre todas la de la seguridad social y tengo que volver a recordar y no son libros inventados

y claro si yo le digo que sobre la seguridad social lo que dice el partido socialista que

como caja única en donde al mismo tiempo se unifiquen los recursos

y que el futuro gobierno del país vasco tendrá capacidad de administración y organización dentro de su territorio de todas las materias relacionadas con la salud y seguridad social bajo la alta inspección del estado

mil novecientos ochenta digo la fecha y

navarro fíjese que involución ha habido un navarro con la configuración de los cuatro territorios y hablando de la seguridad social

es mutación es evolución o es simple y llanamente involución entonces cara a definir el futuro con independencia de que numéricamente se advierta determinado digito

también a otras formaciones por lo menos en vías de consenso de reconocimiento de eso que son pilares para un marco de convivencia desde euskadi y para euskadi que ese reconocimiento del sujeto político y el derecho a decidir y pactar su ejercicio

que habíamos presentado la iniciativa y que teníamos nerviosismo

ninguno ahora preocupación toda porque se habíamos presentado esta iniciativa porque estábamos preocupados por determinadas cuestiones que a nuestro juicio

en la negociación política debiera de dejarse claro y no se estaba dejando después del debate suscitado acerca de esta proposición

todavía mayor se dice por qué se trae aquí esta iniciativa

entre el señor sánchez para formar gobierno puede influir puede influir y mucho aquí y tendremos que dejarlo claro aquí con relación a algunos aspectos

respetar la ley esa es la base y el pilar de la democracia y la constitución

y hay que respetarla y hay determinadas cuestiones que están recogidas en la constitución que a nuestro juicio

pilares básicos en la convivencia y que eso se tiene que dejar

del marco de negociación pero parece que no es así la verdad es que me ha quitado la palabra de la boca señor egibar con relación al partido socialista y luego iré

pero usted también hace escapismo ustedes dicen cosas muy diferentes en esta cámara y fuera de esta cámara en esta cámara disfrazan siempre

como el sujeto político el derecho a decidir la bilateralidad no

lo que dijeron en pamplona ustedes a lo que aspiran es a un reconocimiento

la cuestión está díganlo aquí claramente ese es su nuevo estatus políticos diga claramente aquí lo que dicen

y la cuestión está en si para ustedes darle el apoyo al señor sánchez

lo que no se puede es esconder determinadas cuestiones como que no aparecen en la negociación para que la negociación pueda seguir adelante pero luego fuera de los focos

y mucho en la vida de los vascos y mire

es una cuestión primordial o no es primordial o si renuncian en las negociaciones

que ustedes lo único que quieren es que se completen todas las competencias del estatuto eso es lo que quieren no van a ir más allá

renuncian a querer ese reconocimiento como nación y al partido socialista mire

ninguno yo no sé si es que no sabe dónde está es la nueva frase del partido socialista verdad

al señor iglesias yo no sé me ha dicho usted a mí

que ha hecho usted un ridículo que está haciendo un ridículo solo le diré

un ejercicio de escapismo de disfraz

porque evidentemente saben que con la sonrisa del señor sánchez no es suficiente

las fuerzas políticas le van a pedir algo más y la cuestión está y usted no lo ha dicho si de verdad es asumible lo que nosotros planteamos en nuestra proposición es tan fácil como votarla es tan fácil como votarla señor pastor la cuestión está en si el precio que el señor sánchez además de la sonrisa tiene que pagar para ser investido presidente requiere que lo que está establecido

hay que dejarlo a un lado y eso es lo que usted tiene que decir hoy aquí que eso no se va a dejar a un lado que eso sigue siendo asumible y eso es lo que hay que hacer aquí

a los vascos y al resto de los españoles si de verdad determinadas cuestiones que por lo menos antes para el partido socialista eran innegociables lo siguen siendo y es de lo que se trata es de lo que se trata el resto como su iniciativa es como le digo es a dónde vas manzanas traigo por qué

porque ustedes no se pueden comprometer porque no saben hasta dónde van a ir las cesiones para lograr ser investido

porque no lo saben y por lo tanto como le decía

nerviosismo cero ahora ya se ve que claridad poca porque si de verdad quieren dejar claro que lo que antes consideraban que era indisponible y no negociable lo sigue siendo

si no es que ustedes están cubriéndole el papelón al señor sánchez nada más muchas gracias eskerrik asko

y el pacto de gobierno que se alcance nos afectará directamente a los vascos y por lo tanto es razonable que pueda presentarse una iniciativa

moción que por lo demás compartimos pero que se queda

insuficiente que es defensiva y creo que

en esa moción que nosotros ya digo vamos a votar porque son principios democráticos básicos que evidentemente merecen la aprobación de este parlamento que este parlamento no vaya a aprobar una moción de ese tipo

parlamento al fin y al cabo esta moción habla del respeto a la soberanía nacional

habla del respeto a los procedimientos democráticos y legales para modificar todas las leyes que cada grupo político considere y por lo tanto más allá de que nos parezca

insuficiente nosotros pues vamos a apoyarla yo creo que tal como se ha dicho no es bueno tener miedo en política ni estar nerviosos creo que deberíamos intentar hacer un esfuerzo todos los grupos en presentar cuáles son nuestras propuestas de

nosotros lo hemos venido haciendo durante los últimos años tanto en el congreso de los diputados como en este parlamento y también en esa ponencia

creo que hemos sido suficientemente claros y hemos explicado cuáles son esas reformas que nosotros pensamos que euskadi y españa necesita es decir cuál es digamos

necesitamos para mejorar en definitiva nuestra vida y nuestro bienestar pensamos que hay que reformar el estado pensamos que hay que

el país pensamos que hay que reformar el estado autonómico para suprimir duplicidades e ineficiencias pensamos también que hay que suprimir regímenes excepcionales por el

un derecho basta recordar que aquellos derechos que únicamente disfrutan una parte de la ciudadanía pues no son derechos sino que son privilegios pensamos que hay que recuperar para el estado determinadas competencias claves como la educación

pensamos que hay que suprimir el senado pensamos que hay que suprimir las diputaciones y fusionar municipios pensamos que hay que poner encima de la mesa una serie de reformas

en los últimos años y que a día de hoy pensamos que son urgentes más allá de lo que digan los nacionalistas más allá de la agenda nacionalista

el resto de partidos políticos tenemos que explicar qué es lo que queremos hacer todo ello en todo caso y al menos en nuestro caso para garantizar como digo

hace falta poner en marcha medidas de regeneración de la democracia

hay que reformar las leyes electorales hay que descolonizar la justicia hay que suprimir

o hay que garantizar que el derecho a la información sea un derecho fundamental recogido en la constitución española el partido nacionalista vasco nos dirá que estas no son sus prioridades

de los ciudadanos y creo que debemos dedicar más tiempo a defender estas reformas y estas propuestas que en criticar

hacer los nacionalistas más allá de que evidentemente hay que recordar cuáles son

dice la constitución española por lo tanto no necesitamos ni miedo ni complejos ni inmovilismo hace falta valentía y compromiso para acometer todas esas reformas el señor egibar acusaba al señor pastor de

en la ponencia de autogobierno una propuesta que no es lo suficientemente valiente claro para el señor egibar una propuesta valiente es aquella que tiende a aceptar los presupuestos

yo creo que en este caso y en esta situación política en la que vivimos lo valiente es justo lo contrario lo valiente es no aceptar las propuestas rupturistas de los nacionalistas

es defender la legalidad vigente y defender más igualdad y más bienestar para todos y esto es lo que pedimos también en este

como al propio partido popular entero y al partido socialista que sean valientes que impulsen todas estas reformas y que no acepten
reaccionarios del nacionalismo esto es lo que nosotros pensamos que euskadi y españa necesita urgentemente y a día de hoy eskerrik asko maneiro jauna

señora llanos yo después de oírla me reafirmo en que esto que ha traído usted es un auténtico disparate y una muestra clarísima de filibusterismo político se dice una cosa para hacer la contraria porque una cosa es la letra con la que usted justifica su proposición y otra cosa las verdaderas intenciones que las ha dejado usted palmariamente claras

para salir aquí a hacer el ridículo prefiero que se lo ahorre yo le recomiendo

en política lo peor que se puede hacer es el ridículo lo peor es lo que más le desacredita a uno

si estamos en la situación que estamos entrando en ese tema que a usted le apasiona las negociaciones del gobierno de españa es en gran parte porque el señor rajoy se tiró a la bartola como suele ser su costumbre durante más de cuarenta días sin mover ni un dedo para proponer nada

escudándose en el verbo declinar y el señor sánchez le saldrá como le quiera salir pero por lo menos habrá que reconocerle el coraje y la valentía política de intentarlo de intentarlo con unas líneas que por cierto se han discutido en los órganos de dirección de partido

son conocidas por todo el mundo y que nos pretenda usted aquí hacernos ver como una especie de nacionalistas camuflados de carácter peligroso es poco creíble

en exagerar la nota para ver si así consigue el objetivo le saldrá o no le saldrá

lo habremos intentado e iremos después a unas elecciones con nuestro programa y con la cabeza muy alta cosa que ustedes no podrán hacer porque a lo mejor para esa época no tienen ya ni partido

porque eso sí que me daría a mí bastante vergüenza entre la púnica y la gürtel

más en la sede de valencia yo estaría un poquito preocupado de eso tendrían que preocuparse ustedes y después rápidamente para el señor egibar porque no era el objeto de la intervención ha salido así

le diré que usted no puede pedirnos a los socialistas que nosotros respetemos y defendamos el derecho a decidir porque no creemos en ese fantasmagórico derecho que ustedes proclaman permanentemente

que no está para nada recogido en el espíritu del estatuto de gernika que se pactó en el año setenta y nueve

en la época de los gobiernos de felipe gonzález ramón jaúregui a la sazón diputado socialista del congreso de los diputados les hizo a ustedes una

para la gestión del régimen económico de la seguridad social y ustedes rechazaron aquella propuesta

las políticas penitenciarias se les ofreció a ustedes y ustedes dijeron que no páseme usted este cáliz que menudo problemón se nos viene encima si aceptamos esto y se acabó

con el presidente del gobierno en todo ese tiempo ni en una sola ocasión

jamás fue objeto que se planteara entre los acuerdos que ustedes forzaron en otras materias por cierto bastante mal transferidas algunos capítulos que llegaron a euskadi por lo tanto no me hable usted del pasado porque si quiere usted que nos avergoncemos todos podemos sacar
algunas cosas que ustedes decían el año ochenta en concreto el señor arzalluz eskerrik asko pastor jauna

es nada de la interpretación auténtica auténtica porque hay que calificar como tal

sobre la transferencia de la seguridad social no me dice nada porque para ustedes las cosas prescriben evolucionan mutan

una involución esa es la única realidad y dice que ramón jáuregui ofreció

se han definido también los contenidos de esas materias que nunca este parlamento

nunca ni en seguridad social ni en política penitenciaria nunca

y después viene el partido popular diciendo que estamos con unos atuendos aquí y un disfraz allí y que cuando vamos de asambleas

entonces partido nacionalista vasco partido nacionalista de qué nación la vasca ya lo dice no es ni la española ni la francesa ni la británica ni la escocesa es la vasca estamos hablando de nación vasca y usted sabe cuál es el objetivo fundacional del partido nacionalista vasco que es constituir un estado propio en europa y lo digo

pongo la conjunción adversativa ese es el objetivo ahora no todo el mundo piensa como nosotros por eso creemos que la convivencia entre pueblos hay que buscarla desde el reconocimiento desde el reconocimiento respectivo

para que algo se reconozca hay que respetar y nosotros pedimos ese respeto porque

qué nos ha traído hasta aquí el no reconocimiento efectivo y real de ese sujeto político pueblo vasco y la no asunción de la bilateralidad bilateralidad que por no existir no existe ni en el diccionario la palabra pero sí la relación bilateral pero la bilateral tiene que ser reconocimiento yo también tengo relación bilateral

no no es una relación de igual a igual exige la configuración de sujetos que se respeten con independencia del tamaño de la población

de superficie que tengan eso es lo que estamos pidiendo y a partir de ahí buscar una fórmula de entendimiento no es tan complicado de entender y nosotros no vamos a pedirle ni al señor sánchez ni al señor rajoy ni le hemos pedido nunca que se haga nacionalista vasco que no

nosotros no queremos ni definir ni decidir el futuro de españa que queremos definir y decidir el futuro de nuestro pueblo pueblo vasco nación vasca

pero siendo lo que somos no es tan complicado de entender

nacionalista español debiera entender esta reflexión ustedes dicen que no son nacionalistas igual son una cosa peor son imperialistas

no hombre claro si no asumes las realidades nacionales

que tienes en tu entorno qué eres cuando menos irrespetuoso sí

sí gracias presidenta y buenos días a todos como decía el señor maeztu la política energética empieza a ser uno de esos temas

y sobre el que cada uno intenta aportar lo que cree en la mejor medida que puede formar parte de la solución

y otras en el reclamo de un mayor desarrollo de energías renovables y hoy nos toca hablar de la estrategia energética que el gobierno apunta con el horizonte dos mil treinta lo que también se repite a juicio del grupo socialista es la falta de convencimiento en las respuestas del gobierno

un diagnóstico que nadie se cansa de hacer porque todos lo conocemos todos sabemos cuál es la situación actual de la energía todos sabemos cuáles son las causas de los problemas

ahondan es en el diagnóstico y poco en las soluciones entendemos también que podríamos pactar los diferentes grupos políticos porque creemos que existe voluntad para hacerlo

muchos titulares en torno al desarrollo de las energías renovables y las futuras metas a conseguir hablamos de una estrategia energética hoy

compromisos más importantes hablan de minimizar preservar incentivar promover contribuir pero nunca se habla de plazos concretos de datos numéricos concretos ni de ningún compromiso que vaya más allá

sustantivos como digo verbos que no terminan por concretar nada ayer mismo asistimos a unas comparecencias parlamentarias relativas a la cumbre que se celebró en parís relativa al cambio climático y ahí se habló del verdadero nivel vasco en las políticas

entendemos que el dato está muy lejos de las exigencias europeas

y muy lejos del top ten del que presumía el lehendakari no hace demasiado tiempo

que tenía un objetivo claro pretendíamos escuchar a expertos y científicos que defendían una y otra cosa

la futura política energética de euskadi por eso se creó la ponencia y en eso es en lo que yo creía que estábamos de lo inicial a lo actual un abismo en cualquier caso

porque ha sido incapaz de elaborar una estrategia energética nueva estando el anterior en vigor sin pretender apuntar nada de los que los partidos políticos estamos o pretendemos hacer en esa ponencia una vez más hacer política al margen de todo

eh bildu nos trae una moción consecuencia de interpelación en el último pleno de control asistimos a un debate más o a lo que pretendía ser un debate más

por parte de la consejera tapia y pocos compromisos como digo volvía a insistir en el diagnóstico

que usted siempre aborda este tema ahondando en la importancia del desarrollo de las energías renovables quedándose siempre en el titular

como usted sabe con políticas de mínimos no logramos profundizar en el tema capital del futuro económico de este país que pasa ineludiblemente por el desarrollo

energías renovables usted sabe que todos defendemos las energías renovables

nos molesta lo que tiene que ver con lo solar porque se rompe el paisaje nos molesta instalar energía eólica porque siempre se

que lleve a cabo las energías renovables cuando hay una contestación tan importante como usted sabe siempre ha ocurrido en euskadi cuando se ha intentado implantar por ejemplo el tema de la energía eólica yo misma traje una iniciativa para intentar llegar a un pacto político por la energía eólica

imposible somos una comunidad autónoma capaces de exportar energía eólica a otros lugares tenemos empresas pioneras en las que todo el mundo mira que hace una importante inversión económica para desarrollarlas pero somos incapaces nosotros para poder beneficiarnos de algo que forma parte de nuestro tejido industrial y en el que se están invirtiendo

mucho dinero de las arcas públicas la legislatura está terminando

como le digo sabemos que somos grandes exportadores pero no somos capaces de pactar nada

y nosotros seguimos hablando y hablando bueno hace tiempo que no lo hacemos en esa ponencia energética que pretendía hacer algo

y para justificar la puesta en marcha de una política energética por parte de este gobierno se nos trae una nueva estrategia energética con el horizonte dos mil treinta

sigue en vigor esta estrategia energética para los que nos hemos leído el documento no analiza los logros de esa estrategia que trajo el gobierno lópez entendemos que hubiera sido mejor primero hacer un documento que elaborará qué es lo que se ha conseguido sí efectivamente esa

habló positivamente en ese debate que sí los socialistas trajeron a la cámara

ha cambiado pero el pnv nos trae una nueva se parece mucho muchísimo a la anterior por no decir que es casi calcada y esto no es lo malo lo malo es que no sabemos realmente qué pretende hacer el gobierno vasco con esta nueva estrategia que para nosotros no es más que una escusa para poder demostrar que el gobierno

y desde luego las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios entendemos que no deben ser ignoradas

y desde luego entendemos que todos los grupos plantearemos resoluciones políticas que enriquecerán el documento inicial

y aquí vuelvo a recordar el papel de esta ponencia creo que hay un trabajo adelantado

hemos escuchado al eve pero sería importante escuchar a la señora tapia hemos escuchado a científicos a profesores universitarios

y creo que ese trabajo parlamentario que lleva más de dos años no debiera de ser obviado y mucho menos cuando estamos acabando la legislatura los acuerdos internacionales siguen firmándose siguen ratificándose por parte delos estados que los firman y ahí tenemos la última cumbre

en mi opinión en este gobierno hay grandes palabras en cuanto a la energía grandes discursos y como digo muy poca concreción

un buen punto de partida no porque lo diga yo podemos recurrir a las actas de aquel debate lo dijimos todos los que participamos

el gobierno socialista entendió que los grupos parlamentarios tenían algo que decir y esperamos que después de haber firmado el partido nacionalista vasco la enmienda transaccional efectivamente venga a la cámara y todos

del debate la estrategia que hoy se nos trae aquí probablemente podrá ser mejorada desde luego es un tema que a todos nos importa pero como digo necesita de muchas concreciones para nosotros una carencia fundamental es la falta de profundización en el tema de la pobreza energética habla unas líneas de esto

afectados por este tema un tema que aquí se ha negado más de diez iniciativas

debatido y acordado en esta cámara y el futuro de las renovables como hemos dicho en este país estamos en una situación en las que las exigencias europeas se recrudecen y el documento lo obvia

porque todos sabemos que es un tema polémico y que el señor urkullu ha preferido apartar

que prohíbe el fracking como técnica para lograr el gas y pedimos convencidos una y otra vez el cierre de garoña porque no creemos en la energía nuclear

no queremos el fracking no queremos energía nuclear queremos bajar las emisiones y apostamos por una energía limpia mientras no queremos renunciar a nada y no tenemos planes concretos para nada creo que tenemos algo más que un serio problema los socialistas vascos creemos en la necesidad de un acuerdo para la energía

pero entendemos que hay que empezar a tomar decisiones concretas y a hacer apuestas arriesgadas y claras

la mayoría de las fuerzas políticas de esta cámara somos conscientes

y siempre de la mano del parlamento vasco y no aprobando decisiones al margen del mismo nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

tiene que enseñar la foto completa no una foto parcial si preguntaríamos

a greenpeace a adena le dirían que ya desde marzo

e incluso porque esto venía ya desde como ha comentado la señora rojo

dos mil veinte que hicimos en mayo del dos mil doce comentábamos que había que hacer una revisión de esa estrategia a finales del dos mil catorce

y debido a la crisis económica se establece el desarrollar un nuevo documento pero con la diferencia de las otras dos estrategias que sí que se han traído a este parlamento y esta lógicamente también y la primera estrategia le recuerdo que gobernaba el partido nacionalista vasco la segunda estrategia por el partido socialista y la tercera por nosotros y también viene al parlamento vasco qué se decide y qué tiene de novedad nuevo desarrollo de esta estrategia es que existe la evaluación ambiental estratégica que todos los grupos siempre habíamos deseado que existiese y estos grupos que no sé si es que usted quiere recalcar ese argumento de que apareció en prensa en diciembre lo que se debate en marzo

es qué alcance tiene que tener ese documento de evaluación ambiental estratégica qué alcance tiene que tener si se presenta ese pequeño borrador y es en mayo de dos mil quince cuando ya se decide

y de distintos organismos que han intervenido exactamente el alcance que tiene que tener esa evaluación estratégica de este documento

y ahora como consecuencia de todo ese proceso anterior es en diciembre

a parte de aparecer en prensa como usted dice resulta que también aparece públicamente que es el documento para consulta pública de esta estrategia energética de euskadi y del estudio ambiental estratégico

transparencia toda usted se ha centrado en recalcar algo que es falso

comentando bien luego por qué no trae el gobierno pues porque está ahora para que toda la sociedad lo informe

igual la península ibérica a nivel por la baja interconexión que hay

en el sistema eléctrico europeo y no nos debemos olvidar

y eso lo hemos explicado en esta cámara varias veces de que cuando hay una necesidad de energía lo mismo de alemania y vimos el ejemplo de alemania cuando tuvieron ese fallo

eléctrica viene con lo cual estamos dentro de ese esquema

y yo creo que hoy sí que es cierto que no lo ha traído a colación y es todo el tema de las renovables en esto le vuelvo a decir lo mismo necesitamos

porque llega incluso hasta un treinta por ciento pero con todo el tema eléctrico

pero por favor enseña a la ciudadanía vasca toda la foto completa de alemania que tiene ocho centrales nucleares funcionando hasta el dos mil veintidós están quemando el peor carbón que tienen que es el del nibitor pero qué ocurre pues que es el suyo

está por delante de españa por qué porque está quemando su propio carbón pero qué le ocurre vamos que es tan malo y contamina tanto que sus toneladas equivalentes de ce o dos no mejora

porque ha sido un invierno más favorable con lo cual la foto hay que enseñarla completa incluso alemania por qué

y tiene la responsabilidad de obtener energía para todos ellos y ha decidido por ese modelo ojo que también están empleando fracking en el norte regulado sí pero fracking en el norte también luego quiere trasladar este modelo aquí a euskadi dígalo claro enseñe la foto completa

vascas y vascos a los que hay que ofrecer esa energía entonces hay que tener los pies en el suelo para trabajar por todo ese mundo descarbonizado más renovable siempre vamos a esta ahí

nuestra solidaridad como ha dicho usted con los trabajadores de la acb y es cierto también y hay que dejar los temas en su sitio que

sí que ha dicho claramente que los precios de la energía

se tienen que tomar medidas y de ahí que nuestra propuesta iría encaminada también a que europa

es que tiene una nefasta regulación a nivel del estado español con el tema de la energía

y en este caso de la acb como decía el presidente del comité que aunque también se tienen que tomar medidas ante el elevado precio de la energía lo prioritario es que la unión económica adopte iniciativas

con lo cual eso para también enseñar a la ciudadanía la foto completa

con el tema también

con el tema del porcentaje de renovables necesitamos la foto completa nosotros con iparralde tenemos tres conexiones tres interconexiones una línea de ciento treinta y dos mil otra de doscientos mil y otra de cuatrocientos mil el balance en el dos mil quince es que

estamos continuamente como hemos comentado que es la energía eléctrica es un flujo

pero tenemos un balance negativo que es que hemos absorbido dos mil gigavatios más de francia su apuesta la apuesta de bildu

provienen de la energía nuclear francesa les tenemos que cortar yo creo que no y yo creo que ustedes también están en eso necesitamos ese intercambio y euskadi en ese aspecto está bien interrelacionado a nivel de sistema eléctrico

qué es lo que está ocurriendo incluso a nivel de índices de datos españa está por encima de alemania en cuanto a la accesibilidad

por la ciudadanía alemania nos gana en que tiene más seguridad de suministro porque está quemando su propio carbón nosotros no

en sostenibilidad ambiental alemania está en el puesto cuarenta y cuatro y españa

pero esa es la foto completa de lo que ha decidido alemania nosotros tenemos que volver a recuperar pasaia la central de carbón no

pero con los pies en el suelo en cuanto a pobreza energética volvería a comentar lo mismo es decir señora rojo y señor maeztu veamos la foto completa la foto completa

sobre todo por tres conceptos una escasez de recursos de nuestra propia ciudadanía

y unas viviendas antiguas y de baja eficiencia energética con lo cual analicemos también la foto global de euskadi euskadi

y a la siguiente comunidad le sacamos diez veces más invertimos diez veces más

por que tengan más recursos por que el precio de la energía sea más barato y para eso hay que cambiar la regulación estatal y también por esa eficiencia de los edificios y esas viviendas tan antiguas y hay que trabajar en esa línea en todo eso

fijar el posicionamiento del grupo popular ante esta iniciativa la postura del grupo popular a la moción que presentó bildu es votar no

no hemos presentado enmienda porque entendemos que la iniciativa sencillamente no la merece iniciativa con dos párrafos primeros que dice que se cumpla el reglamento

no entendible y el tercer párrafo como no podía ser de otra manera criticando las múltiples iniciativas que el gobierno de españa ha puesto en marcha en materia energética yo quiero decirles a los señores de eh bildu que desde luego para nuestro grupo o para mí no tienen credibilidad criticando al gobierno de españa ya han demostrado en las últimas elecciones generales que han puesto su voto han dado su voto a otra formación política por lo tanto ustedes han hecho dejación de lo que les correspondía y

de los que no les llegó el mensaje pero desde luego para nosotros no tiene ninguna credibilidad

en la interpelación que quiere un debate en esta cámara sobre

tres años de legislatura no ha planteado nunca un debate ha enredado en el tema energético no ha planteado nunca un debate por lo tanto

y por qué eh bildu no quiere un debate en el tema energético que tanto merodea en el tema energético pues porque no tiene no tienen ni idea ni qué hacer ni cómo les pasa como en el tratamiento de los residuos cuatro años criticando los acuerdos de los demás grupos en gipuzkoa sobre el tratamiento residuos llegan al gobierno y cuál era su modelo

un palo y un cubo ese era su modelo

cuál es su modelo la vela no tienen otro modelo por eso no quiere usted un debate no quieren un debate de energía no les interesa no de la matraca con este tema

lo hubiese planteado pero no tiene ningún interés por lo tanto ahí se acaba su modelo energético en la vela

enreda y enreda y además demuestra un gran desconocimiento

un modelo propio para euskadi excluido del resto como si fuesemos

sabiendo sabiendo o lo debería de saber que producimos

muy pequeñito de lo que consumimos y si no cuál es su alternativa pues la vela no tenemos otra cosa señor maeztu usted nos propone su modelo la vela

estrategia energética como ya dijo la consejera en la interpelación pues lo que nos viene a decir en dos mil veinticinco difícilmente podemos llegar más allá del dieciséis por ciento en producción de energía renovable y por qué dice la señora consejera nadie quiere poner una planta de energía renovable porque la reforma energética del gobierno de españa nos ha hecho mucho daño pero mucho porque nos encontramos en una situación

y señorías la seguridad jurídica no puede consistir en eternizar la fiebre

grupo de empresas verdad para que con las ayudas públicas del erario público

positiva grupo al que se le unieron inversores extranjeros y algunos listos que merodeaban por allá

carísimas primadas con dinero público excesivamente dándoles prioridad

combinado para entrar en el sistema esta juerga nos ha costado a todos veinticinco mil millónes de euros menos mal que llego un cambio de gobierno

todos los españolitos los más débiles y los menos débiles en el recibo de la luz decía el señor maeztu cómo ha subido el recibo de la luz qué cosa oiga entérese que esta juerga la hemos pagado entre todos porque

con dinero público y que me lo paguen los españolitos en el recibo interesante interesante documento

este de les protegía el decreto que se aprobó

y usted quiere que vuelva el lobby este no ahora nos prometen un salto tecnológico este va a ser triple mortal e iremos directamente al pozo y allí

ni el doble de rajoy claro este chollo este chollo verdad que cerró el gobierno del señor rajoy pues sentó muy mal al lobby

no sé cuántos recursos un único inspirador y un único financiador de los recursos vale el doble con cuatrocientos nombres pero así

claro porque españa era un país bananero generaba inseguridad jurídica y entonces se fueron a los tribunales y los tribunales están contestando

y ya dijo el supremo que un negocio que ofrecía rentabilidades por encima del veinte por ciento no debía de vivir del erario público que vamos que con un ocho por ciento

y le rió la razón al gobierno de españa pero claro como el tribunal supremo era una justicia de un país bananero pues era justicia bananera entonces los guays inversores extranjeros que vinieron aquí al chollo pues se fueron a los tribunales europeos

también que ya ha habido un primer pronunciamiento

y ha rechazado el recurso de las renovables y da la razón al gobierno de españa pero es que el tribunal constitucional también se ha pronunciado y avala el recorte de las renovables al considerar que respeta los principios

por lo tanto no hay inseguridad jurídica señor maeztu también para la señora consejera que no se ha debido de enterar y esa es la realidad la pregunta es

por qué no crea un programa de ayudas a las renovables tiene que venir el gobierno de españa a dar subvenciones a las empresas para que inviertan en la comunidad autónoma vasca

muy singular nos decía el señor lehendakari

después del decreto del señor rajoy que euskadi estaría en dos mil veinte en el topo ten de las energías renovables

no le había contado la señora tapia que nos estaban haciendo mucho daño el recorte que había hecho el señor rajoy pues no señor urkullu señora tapia señorías del gobierno ni en el dos mil veinte

no cumplimos el dos mil veinte tenía mucha gracia la señora tapia en la interpelación cuando decía que el veinte por ciento de energías renovables en el dos mil veinte claro ese es un compromiso de los estados que no es un compromiso de euskadi que claro que el estado tendrá que cumplir pero que ella hace lo que puede claro

si quieren tener un estatus de estado como se ha dicho aquí esta mañana que lo quieren tener solo para derechos no para obligaciones es sorprendente

es sorprendente señor

hoy ha hablado aquí una palabra de ahorro energético en la interpelación ni lo mencionó estuvo ayer muy atento usted a la clase de sus dirigentes

no habló de ahorro y eficiencia energética a

no le interesa le recuerdo la energía más barata y más limpia es la que no se consume y la energía eólica es que falta este debate oiga qué problema tres años usted diciendo que falta el debate y aquí el gobierno también nos falta este debate el grupo socialista también uy nos falta el debate qué cosa se nos había olvidado

ustedes no quieren debate porque creo que no tienen ni acuerdo interno de qué hacer con la energía eólica y además es un elemento importante para hacer ruido

que no quiere ruido estamos en la política

pues ahí estamos sin debate siendo el mayor potencial que tenemos para producir energías renovables la eólica por lo tanto señorías menos falsedad menos hipocresía porque ya va tres años de revolver y

brevemente para decir que pues vamos a votar en contra también de la

yo le quiero felicitar al señor carro porque efectivamente ha conseguido que en esta enmienda no haya un solo compromiso para el gobierno vasco punto uno remita la estrategia un ente abstracto no sabemos quién punto dos presente quién presenta

trabaje tiene entidad propia la estrategia no lo sé

esto es serio esto es una broma esto es una
broma ahora el punto cuatro sí eskerrik asko lópez de ocariz andrea el punto cuatro el parlamento vasco insta al gobierno de españa el parlamento vasco insta al gobierno de españa

esto es gracioso qué poca vergüenza qué falta de respeto
esto es pereza o que es esto nada más lópez de ocariz andrea eskerrik asko eskerrik asko

andrea en primer lugar para aclarar una cosa

modelo de alemania y a la capacidad instalada que tiene de fotovoltaica alemania

aquel modelo energético el otro día se lo expliqué a la señora consejera

aquí también lo podemos hacer y aquí tenemos un cero coma dos por ciento y no creo que haya más luz

es por eso y por hacer esa apuesta por las renovables que si se puede hacer en alemania se puede hacer también aquí

que el futuro tiene que ser renovable que la producción energética mejor dicho la transformación porque la energía no se produce tiene que ser renovable

en el modelo energético actual porque también decía la señora rojo

que todos defendemos las energías renovables pero que jamás nos ponemos de acuerdo de dónde hay que poner los molinos del viento igual si

de esa producción energética de esos molinos energéticos como hay en otros lugares instaurando cooperativas

teniendo claro que se benefician ellos también de ese consumo y de los beneficios económicos de esa energía quizás la situación sería diferente porque como he dicho anteriormente no solo es de dónde producimos o de dónde transformamos y cómo transformamos la energía cuáles son las fuentes

sino de quién y dónde se toman las decisiones sobre esa transformación de la energía y voy a poner un ejemplo y lo voy a intentar trasladar con una frase en este momento aquí hay familias

porque hay miseria energética porque hay miserables que dejan en manos de unas pocas empresas las decisiones sobre la energía

por lo tanto hay pobreza energética porque hay miserables también en materia energética y lo que no podemos hacer de las instituciones públicas sabiendo eso lavar la imagen de esas empresas y es hacernos fotos como esta semana como la que nos hemos hecho esta semana el lehendakari y dos consejeros del gobierno vasco con una de las empresas que es culpable de la situación que se vive en la materia energética según se está haciendo esta reunión seguramente

estará dando órdenes de corte de suministro a viviendas de este país y si no lo hace y si no se da el corte de ese suministro es porque con dinero público por medio de cruz roja estamos pagándole las facturas no porque él

a un consumo mínimo energético básico energético y no se puede tampoco tener la cara que en el momento de que tenemos empresas como las que estaban hoy

que tienen que pagar en algunos casos hasta un setenta y cinco más de peaje por acceso a la red este señor con la consejera diciendo que hay que bajar los peajes a la industria vasca cuando es su distribuidora la que cobra esos peajes

para lavar la imagen a este señor de que no puede ser que la factura

esos son los impuestos que le pagamos a este señor por la moratoria nuclear que en su día un gobierno decidió darle a su empresa por gestionar los residuos nucleares del beneficio de sus instalaciones nucleares como garoña

que se llamaron de transición a la competencia que era para que siguieran ganando estas empresas por lo tanto

conseguimos la energía sino cómo hacemos partícipe a la sociedad de esas decisiones y de que tienen derecho a un bien básico como es

gracias presidenta y por ir en orden señor carro

ya le he dicho que hemos hablado del diagnóstico de este tema concreto

al diario de secciones de esta cámara en innumerables ocasiones ya conocemos el diagnóstico

son concreciones por parte de este gobierno qué es lo que quiere hacer en materia energética algo más que vaya con un poco más de compromiso que los titulares que vendemos a los medios de comunicación

en las energías renovables top hamar y estamos en un siete por ciento

creo que este tema es mucho más serio que para hablar con la frivolidad que lo ha hecho la señora lópez de ocariz o señor maeztu en fin me parece que usted huye

solo acudir a la opinión de los ciudadanos cuando nos interesa no se puede y eh bildu tiene una opinión en lo que tiene que ver con las energías renovables que luego no se sustenta

no quieren liarla más de la que está liada con este tema vamos a acudir a los ciudadanos afectados solo en este tema en otros ya décimos nosotros por ejemplo en el tav guipuzcoano

lo contrario por cierto de lo que dijeron muchos municipios guipuzcoanos

por cierto lo que usted ha propuesto en el tema de las energías renovables está en el programa del psoe que ha propuesto el señor sánchez para negociar con las demás fuerzas políticas

por ejemplo pero ustedes en este tema que no tienen claramente no saben qué decir porque ustedes saben que luego son los que no se cogen la pancarta de las plataformas

a ver qué nos cuentan en esto de las eólicas de las solares porque luego ustedes son protagonistas de todas las plataformas que dicen ez

solar ez siempre están ahí y entonces se ven atrapados en este discurso y luego

pero claro yo prefiero quedarme con la política del señor zapatero en este tema que hablar con el primo de rajoy en el tema del cambio climático aquí hay para todos señora lópez de ocariz y usted ha hablado aquí con mucha frivolidad del tema

cuando usted es la única portavoz que no ha hablado del fondo del tema más allá de descalificar las opiniones políticas del resto porque claro usted dice es que no quieren el debate es que no hace falta el debate es que el debate de la energía eólica por ejemplo lo traje yo

en contra ya sabemos que quieren energía nuclear y el resto no

como querían hacer en canarias y el resto de los partidos políticos dijeron que no a ustedes no les hace falta el debate a ustedes lo que les hace falta es el rodillo y esta vez

desde la posición responsable es que haya una ponencia parlamentaria de la que todos formamos parte una ponencia en la que todos nos comprometimos a partir de escuchar a expertos y a políticos

nos comprometimos a debatir para ser capaces de pactar las líneas que marcarán la política energética

si los que estamos aquí estamos en todas las instituciones en las diputaciones en los ayuntamientos en el congreso en el senado estamos en todos los sitios dejemos de hacernos trampas

de los diagnósticos y señor carro hablemos de inversiones qué es lo que van a hacer ustedes en materia porque yo me he leído el documento de la estrategia energética que ahora parece que van a traer a debate al parlamento y no va más allá de proponer fomentar impulsar no eso ya sabemos todos estamos de acuerdo en eso con la foto completa como usted habla

reconociendo la dependencia energética que tiene euskadi respecto a españa respecto a europa porque no vamos a hacernos trampas lo sabemos qué es lo que quiere hacer el gobierno vasco

de plazos de inversiones económicas y de compromisos claros trabajando con el tejido empresarial que tiene euskadi pues seguiremos trayendo y

y está muy bien que hoy pactemos una enmienda en la que el partido nacionalista vasco firma que venga el debate al parlamento pero estaría mucho mejor que el gobierno lo hubiera traído sin pedirlo nosotros incluido usted quiero decir

también dijeron que iban a hacer de uribe kosta el biotopo y no lo han hecho también dijeron que iban a hacer con las dot una cosa y hacen la contraria es que los mandatos parlamentarios

tenemos un problema energético pasa por la energía las soluciones económicas del país entonces pongámonos a trabajar ven todos los foros que nosotros mismos hemos creado usted es el presidente de la ponencia y yo

se va a morir en un cajón y aquí vemos realmente que el gobierno ni siquiera cree en esa mesa de trabajo política donde iban a nacer las líneas que marcaran el futuro de la energía

espero que la enmienda que hemos pactado sirva para algo pero

este gobierno pasa absolutamente del parlamento y punto excepto en lo que le interesa y para lo que le interesa eskerrik asko

me vuelve a sacar las renovables de alemania pero solo las renovables vamos a ver como cualquier persona

su situación es una y es única no podemos sacar ni reconocer mira qué bonito tiene el brazo qué bonito tiene el ojo

y la foto de alemania hoy es muy fea nos comentaba también

mire yo creo que le conviene escuchar las declaraciones del presidente de los trabajadores del acb que la ha tenido hace poco y ese es el que le reconoce que los precios de la energía y esos peajes

esa empresa lo único que hace es trasladar lo que el gobierno del partido popular ha hecho durante los últimos cuatro años y esa es la realidad

respecto a lo que está haciendo este gobierno

seguir apoyando a más de trescientos cincuenta empresas

en la materia de la energía y no solamente eso sino que eso se traduce en hechos

y le voy a contar solamente dos programar a nivel internacional

es el proyecto europeo novamag este es un proyecto europeo que traslada proyecto europeo y son quince centros de europa

y por qué porque estamos hablando del todo el tema de los imanes permanentes para poder dar ese despegue definitivo a las renovables es necesario esos imanes permanentes porque

de lo que llamamos que son las materias raras y que están

ese trabajo a nivel internacional está liderado aquí por una empresa vasca

otro de ese futuro de nuestras renovables el proyecto europeo opera

está coordinado por tecnalia y eve y va a desarrollar una tecnología que permitirá una reducción de costes de operación con todo el tema del mar y con todo el tema de la generación eléctrica

en ese aspecto que también está un poco más retrasado también hay una iniciativa europea también apoyando

nuestras empresas para conseguir esto bien sobre la ponencia de energía es cierto que la última reunión de la ponencia de la energía fue el veintidós de diciembre también es cierto que también se ha quedado también un poco parada

a ningún representante de lo que es el gobierno español y ahora estamos esperando y deseando que haya un nuevo gobierno para cambiar esta política tan nefasta señora lópez de ocariz y esta es la triste realidad sé que hoy usted tiene un marrón pero bueno es que esa es la realidad de cuatro años de este gobierno que en regulación energética

muy mal y no hay una sola empresa que se atreva a invertir aquí en renovables gracias a dios que tenemos un gran tejido empresarial que está trabajando a nivel internacional que está por encima y salvando los muebles gracias a eso porque si tendríamos que estar dependiendo de españa

gracias señora presidenta señor carro estoy orgullosísima de ser del partido popular orgullosísima de mi presidente de partido y de gobierno de españa del señor rajoy estoy orgullosísima

rajoy no puedo estar más orgullosa me enorgullece defenderle tiene alguna duda no porque le puedo dar más datos vale señor carro

y apoyaron el guateque que se montó el gobierno zapatero con unas empresas renovables que esas deben ser fetén deben ser los lobbies buenos y los lobbies malos usted está con los lobbies buenos

los inversores extranjeros que hacen economía circular verdad que vienen captan el dinero público y se piran e invierten fuera eso es lo que usted apoya

que ya vale y aquí si estamos en nuestra capacidad de autogobierno

a tener igual estatus oiga decreto de ayudas de renovables vayan marcándole ah es que no tenemos un euro un problema un problema es que no tienen un euro

no no señor carro señor carro bueno a la señora rojo le quería dar las gracias por darme pie a recordarle porque

una cosa es lo que escribe otra lo que dice y otra lo que hace pero hay algunas cosas que se quedan marcadas para la historia verdad y si hay una es la foto del señor

tres añitos pero le dio tiempo para ir a dallas perfectamente uniformado para hacer la foto de portada

oiga señora rojo de qué va usted pero qué dice

y no ha hablado de pobreza energética no se ha referido hoy quién ha sido el mayor generador

de pobreza energética de que hoy haga sí porque el guateque

todos los españolitos en el recibo mes a mes que hemos acabado de pagarlo ahora y ahora vendrá la otra juerga que es el salto tecnológico

y estos señores apoyarán qué gracia no es que es divertido de verdad

y qué poca lealtad señorías

han aprobado una enmienda de transacción que no obliga al gobierno vasco

a nada va a venir la estrategia por su propio pie aquí y nos va a contar

de verdad pero qué han firmado pero qué leen ustedes pero qué

egutegi legislatiboa betetzeko orduan este gobierno el gobierno vasco tiene un suspenso claro y rotundo en el cumplimiento de su calendario legislativo estamos hablando del cómputo de leyes

que es un indicador claro para valorar la gestión de un gobierno no voy a traer aquí a colación las palabras de enrique lucas murillo que ya las

tuvo ocasión de escuchar decía muy claramente

eta honako egoera hau adierazten dugu los hechos son claros

panorama en relación a la acción de gobierno en relación al cumplimiento de los compromisos en materia legislativa por parte de este gobierno

de los veintinueve proyectos de ley que se contemplaban en el calendario legislativo el señor erkoreka es cierto que hablaba de nueve hacía una pequeña trampilla porque sumaba a los cinco aprobados en relación al calendario legislativo cuatro más el señor erkoreka nos sumaba el de las medidas extraordinarias

pagas extras el de porque se aprueban los presupuestos los proyectos por los que se han aprobado los presupuestos dos mil catorce dos mil quince dos mil dieciséis teniendo en cuenta

los cinco proyectos de ley leyes actualmente en vigor contempladas en ese calendario legislativo son

la ley para la prevención y corrección de la contaminación del suelo la ley del estatuto de las mujeres agricultoras

teniendo en cuenta que estos dos últimos como bien recordará el señor erkoreka se aprobaron en el último pleno del anterior periodo de sesiones es decir el veintitrés de diciembre de dos mil quince hay que recordar aquí también los proyectos de ley que han sido retirados uno llegó a esta cámara el proyecto de ley de la administración pública pero en el último momento este gobierno

no sufrir una derrota evidente por su falta de cintura

esencial tuvo que retirarlo como digo en el último minuto otros dos proyectos de ley el gobierno vasco ha renunciado a su remisión

de los que están en tramitación nueve han llegado en el último año por lo tanto el retraso es

en la que estaba prevista que se remitieran esos proyectos de ley a la cámara y la fecha en la que han llegado

nos decía que el plazo de elaboración de un proyecto de ley en el gobierno de acuerdo a toda la tramitación interna que tiene que seguir un proyecto de ley es de un año viendo que los nueve proyectos de ley han llegado en el último año está claro que ustedes han estado algún tiempo dormidos y de los que están en tramitación veremos cuantos se aprueban en este periodo de sesiones que por cierto es el último de la legislatura teniendo en cuenta que faltan cinco meses

todavía no se han sustanciado las respectivas comparecencias y está muy verde el inicio de la tramitación del debate

en la ponencia tras la presentación de enmiendas de acuerdo a la última actualización del calendario legislativo

febrero hay proyectos de ley que podemos decir claramente que no van a venir a este parlamento

el proyecto de ley vasca de empleo que ya el gobierno ha renunciado a su remisión el proyecto de ley de cooperativas de euskadi proyecto de ley también demandado en numerosas ocasiones en este parlamento proyecto de ley de subvenciones y ayudas a la comunidad autónoma de euskadi proyecto de ley de modificación del decreto legislativo

el régimen presupuestario aplicable a las fundaciones consorcios proyecto de ley de metodología de distribución de recursos y determinación de las aportaciones en las diputaciones forales

de ley de documentos y archivos de euskadi proyecto de ley sobre el ejercicio de profesiones del deporte del país vasco

y proyecto general de protección del medio ambiente al que antes he hecho referencia todos estos proyectos de ley son los que están contemplados en esa relación de veintinueve proyectos de ley

no han llegado al parlamento y obviamente mucho nos tememos que no van a llegar y en el caso de que lleguen todos ustedes comprenderán señorías que es muy difícil que lleguen a ver por lo tanto como decía el panorama es bastante desolador por calificarlo de alguna forma son once de esos veintinueve los que todavía no han llegado que son los que acabo de señalar como ya manifestamos en la interpelación que contestó el señor erkoreka y no el señor lehendakari al que iba formulada la misma

incumplimiento de la palabra dada por el propio gobierno y por el propio lehendakari cuando en reiteradas ocasiones

se nos decía por parte del lehendakari que se comprometía a la presentación y aprobación de veintinueve proyectos de ley durante la presente legislatura

este gobierno incluso ha mostrado un desprecio a este parlamento cuando hay mandatos

al gobierno vasco a que acelere la tramitación de los proyectos de ley pendientes y sobre todo proyectos de ley concretos como puede ser el proyecto de ley de cooperativas

otro más podemos decir por lo tanto que este gobierno se ha saltado los requerimientos

del calendario legislativo no presentando todavía muchos

incluso otros que se han reclamado llegando con un evidente y constatado retraso y perdóneme señor erkoreka que es el que está aquí usted como miembro del gobierno presente me hubiera gustado que hubiera estado el lehendakari porque me parece un debate importante para medir

y la acción de gobierno con este panorama que hemos descrito

no valen interpretaciones aquí los hechos como he dicho anteriormente son claros rotundos y poca discusión

y usted cuando me contestó el otro día a la interpelación volvió

balones fuera depositando la responsabilidad de que no haya un número suficiente o adecuado

como gobierno en cuanto a la acción legislativa que se ha impulsado digo que depositaba la responsabilidad en el parlamento vasco

pero desde luego si alguien tiene responsabilidad es el gobierno que no ha tenido la celeridad adecuada en la remisión de los proyectos de ley al parlamento vasco

remitido en el último año a parte de los once que todavía no se han remitido y por otra parte cuando un gobierno

suscitó mucho interés no tiene las mayorías suficientes tiene que buscar las mayorías suficientes porque si no se encuentra

de administraciones públicas por lo tanto vuelven a hacer un ejercicio de escapismo vuelven a echar balones fuera parece ser que todo el mundo tiene la culpa

los recursos humanos para legislar sí que es cierto que la oposición

indudablemente la actividad legislativa en nombre propio al que corresponde es al gobierno porque ya digo que es el que se supone que tiene que impulsar esa actividad también es cierto que en esta cámara nos hemos encontrado con

populares impulsadas por los ciudadanos también en materias muy sustanciales por la inacción también

gobierno por lo tanto se han incumplido los compromisos adquiridos los que ustedes han adquirido como gobierno y el propio lehendakari lo que demuestra es una clara inacción de este

un gobierno que demuestra una pasividad un gobierno que parece que se guía por el curso de los acontecimientos se fía al curso de los

adjetivos que yo creo que vienen muy bien a cuento ante la evidencia de los hechos como es un gobierno apático pasivo anestesiado y desde luego que toda esta pasividad demuestra una clara de ambición y de dónde están las verdaderas prioridades de este gobierno nosotros hemos presentado la moción una moción en la que obviamente constatamos esa pasividad del gobierno vasco denunciamos esa pasividad del gobierno vasco en el cumplimiento del calendario legislativo y luego nos parecía importante

la idea de volver a instar al gobierno a que dé celeridad a la tramitación de los proyectos de ley pendientes y obviamente priorizando aquellos que son más relevantes de cara a resolver los problemas reales de los ciudadanos

de la cámara viendo las enmiendas presentadas hemos llegado a una enmienda de transacción que yo creo que es un acuerdo importante que deja de nuevo en evidencia a este gobierno en relación al reiterado incumplimiento del calendario

yo desde luego agradezco la colaboración y que va a ser posible por lo tanto instar de nuevo algobierno en esta materia y esperemos que ya de una vez por todas se ponga las pilas aunque como sucede con los exámenes ya el alumno desde luego no va lo suficientemente preparado y desde luego el examen está claro que no se va aprobar lo único a ver si en vez de tener un suspenso rotundo logra llegar

ni van a llegar yo espero que también los grupos que no han presentado enmiendas me estoy refiriendo a eh bildu zuzenketak ez ditu aurkeztu suposatzen dut

sí gracias presidenta hemos firmado una transaccional los tres grupos pero tengo que reconocer que es una

corta porque al parecer ha habido algún grupo que ha decidido no incluir la denuncia en relación al incumplimiento evidente del calendario legislativo por parte del gobierno tanto la iniciativa original como la enmienda del grupo upyd hablaban denunciar el incumplimiento del calendario legislativo pero al parecer el grupo socialista ha preferido sustituir este verbo por el de constatar y yo creo que este parlamento debe decir algo más que constata

este parlamento debería denunciar que este gobierno ha incumplido los plazos que estableció al inicio de la legislatura en todo caso creo que

del grupo socialista la señora garrido ha hecho un

los hechos tal como han sido efectivamente han sido aprobados únicamente cinco proyectos de ley durante estos tres años de legislatura

la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas la ley del plan vasco de estadística dos mil catorce dos mil diecisiete la ley de modificación de la ley de elecciones al parlamento vasco

pero en todo caso solamente han sido aprobados esos cinco proyectos de ley durante estos tres años y evidentemente el gobierno

a la hora de presentar los proyectos de ley sino que también tiene responsabilidad a la hora de que se aprueben porque se supone que cuando se presenta un proyecto de ley el gobierno cuenta el apoyo supuesto de otros grupos o así al menos debería ser pero en todo caso ya digo que solamente han sido aprobados cinco proyectos de ley además se retiró la ley de administración pública y se ha suprimido del calendario legislativo una ley tan importante y necesaria vasca de empleo y también ha sido retirada la ley general de protección del medio ambiente de la comunidad autónoma del país vasco en relación a la ley de aportaciones ni está ni se le espera podemos ir analizando proyecto por proyecto para poner de manifiesto no solamente constatar sino denunciar

por parte del gobierno del calendario legislativo que presentó en su momento la ley de actividad comercial tenía previsto el gobierno presentarla

se registró el dieciséis de febrero de dos mil quince la ley de protección de los animales se supone que iba a presentarse durante el primer semestre de dos mil catorce

ni siquiera ha sido presentada a día de hoy la ley municipal de euskadi se iba a presentar

se registró a finales de ese mismo año la ley de administración pública se presentó fuera de plazo estaba prevista su presentación durante el primer semestre de dos mil catorce y se presentó tarde además después al no contar con los apoyos suficientes fue retirada la ley de modificación de la ley de

la ley de fundaciones del país vasco se iba a presentar durante el segundo semestre de dos mil catorce se registró

el veinte de julio de dos mil quince la ley de ordenación del servicio jurídico del gobierno vasco se iba a presentar el segundo semestre de dos mil catorce se registró

se presentó a inicios del año dos mil quince la ley de adicciones se iba a presentar durante el segundo semestre de dos mil catorce y se registró ya en dos mil quince

y se ha registrado recientemente en este parlamento la ley de

de dos mil quince se registró durante el segundo semestre de dos mil quince la ley vasca de empleo

hace un año no se ha presentado y finalmente se ha retirado del calendario legislativo la ley de modificación de cajas de ahorro se iba a presentar durante el primer semestre de dos mil quince se presentó durante el verano de dos mil quince

se iba a presentar durante el segundo semestre de dos mil quince se presentó en dos mil dieciséis y en fin con la práctica totalidad de cada uno de los proyectos de ley algunos no se van a presentar otros

se han presentado fuera de plazo y muchos de ellos no solamente fuera de plazo si no en fin

conclusión de todo esto evidencia incumplimiento fragante

el gobierno vasco no basta por lo tanto con constatarlo hay que denunciarlo de ahí nuestra enmienda por eso proponíamos que este parlamento denunciara

reiterado del calendario por parte del gobierno así como su inacción política en iniciativas políticas esenciales para los ciudadanos vascos y por eso proponíamos instar al gobierno a dar celeridad a la remisión de los proyectos de ley pendientes y a dar prioridad a la acción relevante y útil para los ciudadanos dejando al margen otros debates estériles a día de hoy no se ha reformado tampoco la ley de territorios históricos que consideramos que es una ley que debe reformarse

interpuestos por varias diputaciones y tampoco se va a terminar de reformar esa ley de territorios históricos tampoco tenemos una ley de transparencia cuando faltan unos meses para la finalización de la legislatura ni tendremos una ley de empleo ni se ha reformado la ley electoral como se debía haber reformado se han introducido una serie de parches pero

de lo que se tenía que haber reformado tampoco se ha reformado la ley del tribunal vasco de cuentas públicas para despolitizarlo y profesionalizarlo

para redimensionar la institución el gobierno podía haber presentado sendos proyectos de ley no quiso hacerlo tuvieron que ser otros grupos los que presentaran estas iniciativas a día de hoy todavía estas modificaciones legales no se han llevado a cabo

a los grupos políticos en una actitud que nosotros consideramos absolutamente vergonzosa porque obvia que ha incumplido la práctica totalidad de los plazos

estos proyectos de ley o su debate se puedan alargar en el tiempo lo cierto es que se han presentado prácticamente todos los proyectos de ley tarde digamos fuera de plazo lo que va a hacer que algunos proyectos de ley pues no se vayan a aprobar de esta legislatura por otro lado gracias a los grupos parlamentarios se aprobó la ley de vivienda seguramente la ley más importante aprobada

y con los votos de la oposición y también se aprobó la ley de custodia compartida a iniciativa de la propia sociedad vasca a través de una ilp

al parlamento pero la responsabilidad señor erkoreka

no hay que analizar solo las leyes aprobadas que también sino los proyectos presentados ante esta cámara y el momento en que se presentaron por cierto

la no reforma del reglamento del parlamento vasco como consecuencia de que la señora presidenta no convoca la correspondiente comisión

supongo que como consecuencia de un pacto opaco entre distintos grupos políticos nosotros presentamos nuestras iniciativas

ciento tres iniciativas para proceder a reformar el reglamento del parlamento vasco durante el último año y medio esa comisión

dos veces por lo tanto en fin aquí las responsabilidades son varias y todas ellas tienen un solo color político que es el color político del partido nacionalista

sino que denunciamos el incumplimiento del calendario legislativo por parte del gobierno el cual ha preferido insistir en debates estériles

ese es el resumen los hechos son evidentes incumplimiento fragrante y por lo tanto nuestra denuncia ante estos hechos

gracias presidenta bien este asunto no es la primera vez ni mucho menos que se trae

porque ciertamente la diligencia la rapidez la iniciativa como características no son precisamente las que adornan a este gobierno salvo en un ámbito en el que hay que reconocer que son sin diligentes el de la publicidad y el autobombo

lamentablemente no se puede decir lo mismo de las distintas tareas que constituyen la acción de gobierno basta recordar por poner encima de la mesa los propios compromisos de gobierno cuáles eran los tres ejes estratégicos que definió para esta legislatura afianzar la reactivación económica y el empleo

y comprobar luego lo que se ha hecho en lo último desde luego más bien poco porque el gobierno ha pretendido que sean los grupos parlamentarios los que les haga el trabajo

lo mismo ocurre con el ámbito de la gestión del fin de eta aunque las responsabilidades aquí están algo más repartidas mucho plan mucho estudio pagado

y en lo que se refiere a la reactivación de la economía y el empleo pues qué quieren que les diga y eso que el gobierno ha contado con la colaboración responsable del partido socialista

recursos económicos procedentes de la reforma fiscal incluida en el acuerdo de país que firmamos en el dos mil trece e ideas además para llevar a la práctica programas concretos

pero desde luego si hay un ámbito en el que queda reflejada fielmente la pasividad de este gobierno

de su propio calendario legislativo esto no fue una imposición del parlamento nunca lo es es una responsabilidad del gobierno presentar el calendario son sus propios compromisos y ellos mismos marcan los plazos en tres años y tres meses que llevamos de legislatura se han aprobado en este parlamento

parece que es bastante presentable pero de ellas solo la tercera parte corresponde a proyectos presentados por el gobierno y desde luego no han sido precisamente los de mayor trascendencia e impacto público si dejamos fuera la aprobación de los presupuestos han salido a delante más iniciativas legislativas promovidas por el grupo socialista que las impulsadas por el propio ejecutivo

en este momento tenemos en tramitación en la cámara veinticuatro proyectos de los que catorce han sido presentados por el ejecutivo nueve por los grupos de la oposición y uno por iniciativa popular no parece a estas alturas un balance muy lúcido

y el gobierno lo sabe perfectamente como lo sabe el partido nacionalista vasco

está embarcado en crear una espesa cortina de humo con este asunto por un lado trata de acelerar la remisión de proyectos de ley

porque ya ni hay tiempo ni capacidad legislativa y como los malos estudiantes

la segunda estrategia endosar el resultado de su falta de diligencia a este parlamento a los grupos parlamentarios de la oposición

porque tiene gracia que con estos antecedentes el lehendakari traslade a la cámara la responsabilidad de aprobar leyes que algunos casos ni siquiera ha remitido a este parlamento y además

y menos deliberación son palabras textuales y eso se lo dice a una cámara parlamentaria cuya una de sus principales funciones es precisamente la deliberación entre otras cosas de los proyectos legislativos pues

no delibere no opine y apruébeme lo que yo le traigo a la cámara es lo que nos viene a decir el lehendakari son palabras textuales de él que me parecen

y tiene triste gracia que lo haga un gobierno que se vio obligado a retirar con nocturnidad unos presupuestos porque no había trabajado los apoyos necesarios para aprobarlos

que ha desistido de un proyecto de ley de empleo creando por cierto un incendio entre el actual consejero y el anterior o que vende para junio otro proyecto

a este parlamento y todavía tiene más gracia que se hagan llamadas a activar el trabajo legislativo desde una formación que en un pasado nada lejano trató de bloquear

para paralizar la tramitación de la iniciativa para revisar la ley de territorios históricos aquí se ha recordado que una de las leyes más importantes

cuánto tiempo estuvo dando vueltas por este parlamento la ley de vivienda retrasada entre otros por el partido nacionalista vasco para que no llegara a aprobarse casi tres años casi tres años señores del partido nacionalista vasco una de las leyes más importantes que se ha aprobado en este parlamento es verdad que al final tuvieron que decir que la ley la hacían suya

tal ley en este parlamento y vamos a entrar también en la ley municipal saben usted cuándo presentó el gobierno el proyecto de ley municipal

casi dos años después de haberse constituido este parlamento y no fue ni por falta de textos previos ni por falta de textos mejores que el que llegó y este es el segundo proyecto más temprano de los catorce que tienen en tramitación y ahora claro vienen las prisas en su moción el grupo popular

algo en lo que casi todos los grupos estamos de acuerdo y en un segundo punto le insta a que dé celeridad a la revisión de los proyectos de ley pendientes

de legislatura pedirle esto al gobierno no solo es una redundancia sino que es un ejercicio estéril

y su capacidad porque aprobar lo que espero que aprobemos hoy ya es una denuncia suficientemente contundente en primer lugar

que hay que ser constructivos y por eso planteamos que el gobierno diga a este parlamento cuáles de esos proyectos de ley que en teoría

se consideran de aprobación prioritaria porque son especialmente importantes para la ciudadanía o porque afectan a un mayor número de ciudadanos para ordenar mejor los trabajos de la cámara

les invitamos también a que en vez de levantar cortinas de humo ventilar culpas defina de verdad esas prioridades y nos diga cuáles son esos seis u ocho proyectos

son palabras del señor egibar hace solo unos días lo ponía encima de la mesa de forma muy realista

posibles aprobar para intentar sacarlos adelante y eso es lo que pedimos que el gobierno nos concrete prioridades

valorar las tareas pendientes centrar los esfuerzos en los proyectos que de verdad

con rigor y con responsabilidad no sea que nos pase como con algunas iniciativas ahí tenemos desde in illo tempore la ponencia de duplicidades durmiendo el sueño de los justos

ahí tenemos también alguna otra propuesta como la ley de fundaciones donde hay

de las que nada se sabe nunca se convoca no se les cita y por lo tanto los trabajos se paralizan
un interés en paralizar la actividad parlamentaria eskerrik asko pastor jauna

sailburua legebiltzarkideok egun on denoi empezaré diciendo que este gobierno al parecer es suspendido por casi todos ustedes pero quien no le suspende es la ciudadanía señora garrido

nos encontramos ante una iniciativa que no puedo tener más que una valoración absolutamente negativa

en línea con la acción política del gobierno del estado que demuestra la incapacidad del partido popular para realizar políticas

y acuerdo y de aportar en positivo esto también es aplicable para la transacción que han firmado y que ha empeorado con mucho la enmienda del partido socialista la crítica al gobierno no solo es legítima

lo que no es aceptable es la falta de rigor y el desconocimiento que muestra la proponente veamos el porqué de esta afirmación nos dice la proponente que de los veintinueve proyectos de ley que figuran en el calendario legislativo del gobierno

mezcla la iniciativa legislativa del gobierno con el número de leyes aprobadas dando a entender que el gobierno solo ha aprobado cinco proyectos de ley cuando en realidad el consejo de gobierno ha aprobado veintidós de los veintinueve proyectos

y el resto están en tramitación esto aparece en la propuesta confunde la aprobación de los proyectos de ley es decir la iniciativa legislativa del gobierno con la aprobación de las leyes por el parlamento de ahí que solo le salgan cinco

que son lo que corresponde a la iniciativa legislativa del gobierno y que pide priorizar en su moción

toda la confusión la realidad

segundo insta al gobierno a dar celeridad a la remisión de los proyectos de ley pendientes dando así prioridad a la acción legislativa debiera de conocer

de ley conllevan un procedimiento aprobado por ley de este parlamento por lo tanto la petición de celeridad no tiene sentido puesto que los proyectos se envían cuando son aprobados siguiendo el procedimiento legalmente establecido todos los proyectos pendientes de remisión están inmersos en dicho procedimientos y será cuando este finalice cuando serán remitidos de ahí lo extemporáneo de la petición realizada tanto en la moción como

en este punto quiero realizar un par de reflexiones señora garrido aquí no existen los decretos leyes que tanto gustan al partido popular y que permitirían saltarse el referido procedimiento el nuestro es un procedimiento democrático y participativo otra diferencia

y que no se cambien a toda prisa cuando cambie la relación de fuerzas parlamentarias como sucede en el caso del pp

cierto en algunos casos alargar los plazos de inicio del procedimiento de aprobación cuidamos también a diferencia de ustedes la seguridad jurídica

en términos cuantitativos leyes a peso pero de baja calidad de modo que luego los tribunales digan por ejemplo que la utilización de los decretos leyes no está justificada como es el caso de muchos de los aprobados por el partido popular por otro lado

es porque consideran que hay tiempo suficiente para su aprobación algo con lo que coincidimos plenamente tanto más en el caso de los ya aprobados y remitidos

si realmente lo que le preocupa es la acción legislativa

en la aprobación de los quince proyectos ya remitidos porque lo que no es de entender es que se haga una propuesta

de proyectos de ley que luego consideren que no se vayan a aprobar espero que esto lo puedan explicar un poquito mejor después de lo que ha dicho hoy porque sino

con esto demuestra señora garrido un absoluto desconocimiento de que de lo que es el poder ejecutivo ya que dice dando así prioridad a la acción legislativa frente a otros debates estériles que no representa los intereses de los ciudadanos vascos

tiene otras funciones fundamentales igual de importantes que la de iniciativa legislativa el gobierno tiene al igual que el parlamento la función de la iniciativa legislativa

que el parlamento tiene la función exclusiva de aprobar las leyes el gobierno es el poder ejecutivo y su acción gubernamental es la que justifica por ejemplo la función de control de este parlamento algo que a estas alturas debiera usted de tener claro

le voy a dar algunas pistas que le puedan ayudar a comprender la separación de poderes en un estado democrático de derecho algo que comprendo que se le haga un tanto difícil

y en las cámaras legislativas voy a las pistas las seiscientos veintinueve iniciativas y los catorce planes estratégicos recogidos en el programa de gobierno se están desarrollando como no puede ser de otro modo en este trámite no puedo profundizar en el cada uno de ellos pero al menos

en que consiste en parte la acción de gobierno plan de paz y convivencia

plan de internacionalización plan de industrialización plan de innovación pública

plan de seguridad pública plan vasco de formación profesional cuarto programa marco medioambiental plan de ciencia tecnología e innovación plan universitario plan estratégico de servicio sociales con seiscientos veintinueve iniciativas esto es posibilidad como dicen ustedes en la acción política como dicen en la transacción pues bien creo que no entienden

de gobernar yo comprendo que entre su confusión ante los conceptos básicos que le he señalado y su obsesión

plantea una iniciativa tan en negativo y carente de fundamento

en su enmienda insta al gobierno a que señale los proyectos de ley que considera de tramitación prioritaria yo le diría que el gobierno considera todas las leyes importantes

quince proyectos remitidos y en trámite en este parlamento por lo tanto material si quiere ya tiene por dónde coger y por dónde trabajar dicho esto el motivo de tener que priorizar salvo que este anunciando de ante mano que se va a vetar tal y como ha hecho la señora garrido la aprobación de un determinado número de proyectos de ley

usted ha puesto en duda en principio espero que

de estas intervenciones porque claro si

para qué piden remitir con celeridad los proyectos pendientes no sé qué sentido tiene esto en una aportación positiva

con una visión de país que tiene que tener este parlamento a la hora de aprobar las leyes y de priorizar cuáles son las leyes más importantes no acabo de entender sinceramente espero que me lo explique en la siguiente intervención

de que hay tiempo más que suficiente para poder aprobar todos los proyectos del calendario tal y como lo reconocía en su propuesta inicial tanto la señora garrido como el señor maneiro aunque hoy

enmienda que ha hecho usted bien pero no solamente es una cuestión de opinión de los grupos sino que les voy a dar unos datos que lo dejan meridianamente claro

me voy a remitir a los datos reales de la anterior legislatura cuando gobernaba el partido socialista plazo de aprobación de las leyes en este parlamento en el anterior legislatura tres leyes se aprobaron

dos en cinco meses desde su entrada cuatro en seis meses desde su entrada dos en siete meses desde su entrada otras dos en ocho meses

una en diez meses dos en once meses otra en doce meses no incluyo presupuestos si nos remitimos

se han llegado a aprobar en cuatro meses pasando por las dos cámaras para que quede el dato por lo tanto no es posible alegar falta de tiempo

para aprobar los proyectos de ley tanto los ya remitidos muchos de los cuales

con plazos superiores al año y medio y dos años y el que menos diez meses de los que están remitidos

que tendrán y en cualquier caso también los que se vayan a remitir como mínimo tendrán un plazo

estos son a día de hoy las previsiones que podemos realizar sobre bases objetivas honek erantzuten du bil duk egindako galderari epeei buruz en cualquier caso hay quince proyectos de ley remitidos a esta cámara y por lo tanto ahí tenemos donde trabajar sin necesidad alguna de entrar en priorizaciones porque si es por tiempo tiempo hay de sobra para aprobarlas todas ellas bukatzeko zer aukeratuko duzue

iniciativa no le haya gustado al partido nacionalista vasco y a este gobierno porque

acción legislativa de este gobierno yo lo leí y lo vuelvo a traer hoy aquí a colación lo que decía el señor enrique lucas murillo que una muestra de la importancia política de la iniciativa legislativa gubernamental

y su aptitud y que el cómputo de leyes aprobado cada año es por eso un índice habitual para valorar la gestión gubernamental de modo que cuando no se presentan proyectos de ley con el ritmo o la intensidad demandada por los grupos políticos representados en el parlamento o su contenido

se concluye que el gobierno el gobierno y no la oposición no cumple su misión la iniciativa legislativa gubernamental adquiere así una significación

enredarnos en esta cámara cuando los hechos son tozudos son rotundos son incontestables

en evidencia a este gobierno cinco de veintinueve en el calendario legislativo venían veintinueve proyectos de ley

ha remitido una serie de proyectos más que todavía están en tramitación pero aprobados han sido cinco

los cuatro los que le he dicho el de las pagas extras y los tres de presupuestos pero de los que venían en ese calendario legislativo son cinco de veintinueve y según la información que ustedes han remitido a este parlamento todavía quedan once sin traer y once que todavía no han llegado y no sé usted dice

no sé cómo mide el tiempo en la actividad

en el gobierno tarda en su elaboración

con todos los medios que tiene el gobierno recursos instrumentos tardan un año y ustedes qué quieren que aquí en el parlamento vasco los grupos parlamentarios

a los ciudadanos a los que representamos o sea que el gobierno tiene que tener tiempo suficiente pero los grupos en esta cámara para trabajar tenemos que hacer visto y no visto casi con los proyectos de ley que nos remite este

remitidos en el último año nueve de los que han sido remitidos han sido en el último año y eso que el señor erkoreka nos volvía a decir ya lo siento y si me hubiera contestado el lehendakari le hubiera citado en esta intervención más

del gobierno vasco y es el que se comprometió además a la remisión de los veintinueve proyectos de ley pero los hechos son los que son los hechos son que ustedes no han hecho los deberes que ustedes han estado haciendo otras cosas pensando otras cosas y muchos planes me dice muchos planes

dos iniciativas concretas para instarles a raíz de un plan aprobado en este parlamento dos iniciativas concretas para instarles a remitir dos estrategias que ustedes

propaganda y pura propaganda que se queda en el papel y que ustedes luego son incapaces de llevar a la práctica y que este parlamento

por lo tanto menos balones fuera menos escapismo ustedes asuman su responsabilidad claro es que otros gobiernos han asumido su responsabilidad ya sé que el gobierno de españa y bueno parece ser que ahora que ha sido presidido por el gobierno

cómo hacen los proyectos de ley y cómo se aprueban las leyes pregúnteles doscientos cuarenta pero es que ustedes cinco cinco

resumidas cuentas escapismo balones fuera para topar sus propias carencias y asumir su propia responsabilidad que en este tema es la suya la del gobierno y la del partido que apoya al gobierno el gobierno porque haya remitido los proyectos de ley que las ha remitido tarde

absolutamente infumable y luego el grupo que apoya al gobierno también tendrá alguna responsabilidad que son veintisiete

en definitiva hoy un tirón de orejas a este gobierno en este acuerdo que espero que salga adelante yo sí que quiero agradecer a todos los grupos que van a votar a favor del mismo y que deja muy claro desde luego el incumplimiento de los compromisos de este gobierno y la dejación absoluta de su responsabilidad en la acción de gobierno
manifestada en la previsión legislativa que solo le corresponde a este gobierno eskerrik asko garrido anderea mistoa

es una iniciativa que debe recibir una valoración negativa

lo que hacemos es nuestra labor la labor que nos corresponde como grupos políticos de este parlamento la labor de controlar al gobierno

y es evidente que el gobierno ha incumplido claramente el calendario legislativo y que nos acuse de falta de rigor en fin es un esperpento que solo puede estar protagonizado por el señor arieta habla de falta de rigor hombre falta de rigor la suya y además con altas dosis de prepotencia y manipulaciones varias

evidente hemos explicado las razones que justifican esta argumentación y estos hechos es evidente estamos hablando de presentación de proyectos de ley por parte del gobierno vasco fuera de plazo fuera del plazo es decir de manera tardía estamos hablando de otros proyectos de ley que no han sido presentados y como consecuencia de que no han sido presentados no van a ser aprobados

retirados finalmente por parte del gobierno vasco esto es innegable y evidentemente el gobierno vasco también es responsable de que no se aprueben

de ley remitidos por este gobierno puesto que es responsable de que con carácter previo trate de tejer complicidades entre los diferentes grupos políticos y trate de llegar a acuerdos si no consigue esas complicidades y no consigue los acuerdos suficientes demuestra evidentemente en minoría y por lo tanto incumple a su vez el propio calendario legislativo pero no confundimos el trabajo del gobierno vasco con el trabajo del parlamento vasco lo distinguimos perfectamente yo al menos los distingo

del gobierno vasco y otra cosa es el trabajo de este parlamento pero hemos hablado principalmente del trabajo no realizado por parte de este gobierno además el señor arieta poniendo escusas recuerda el procedimiento que debe cumplir cada

por el consejo de gobierno y antes de remitirlo a la cámara evidentemente hay un procedimiento que debe respetarse pero este procedimiento ya lo conocía el gobierno vasco cuando decidió elaborar ese calendario legislativo por lo tanto el incumplimiento de este calendario legislativo yo le he dado datos cinco proyectos de ley que han sido aprobados por este parlamento pero no solamente he dicho eso

han sido presentados fuera de plazo de manera tardía muy fuera de plazo en algunos casos meses después del compromiso

más de un año y eso es responsabilidad exclusiva del gobierno vasco además se retiró la ley de administraciones públicas y se ha suprimido del calendario legislativo la ley vasca de empleo y también ha sido retirada la ley general de protección del medioambiente de la comunidad autónoma del país vasco y tampoco ha sido presentada la ley

es responsabilidad clara del gobierno vasco por lo tanto no venga a aquí a intentar engañarnos señor arieta porque los datos son los que son yo

cada uno de estos proyectos de ley y señalar claramente cuál fue el compromiso del gobierno vasco para su presentación y cuándo han sido finalmente presentados teniendo en cuenta además de que algunos de ellos no han sido presentados por lo tanto no manipule

lo injustificable ha habido un incumplimiento claro del calendario legislativo no ponga excusas no acuse a los grupos políticos de entorpecer la labor de aprobación de esos proyectos de ley estamos hablando de la responsabilidad del gobierno vasco y es evidente que esa responsabilidad existe además

no tenemos todavía una ley de transparencia no vamos a tener una ley de empleo no ha sido modificada como se debía electoral es decir el gobierno vasco no ha hecho nada para tener aprobados estos proyectos de ley que nosotros consideramos son importantes para la ciudadanía vasca tampoco ha hecho nada para reformar el tribunal de cuentas públicas tampoco ha hecho nada para reformar la ley del ararteko y

importantes todas ellas han sido aprobadas como consecuencia de la acción política de los grupos de la oposición como la ley de vivienda o como consecuencia de la acción política de la propia sociedad por ejemplo la ley de custodia compartida por lo tanto reconozca estos hechos

al resto reconozca los errores cometidos y evidentemente

no van a votar a favor de esta transaccional pero es una transaccional que tiene todo el rigor del mundo y que lo que trata en última instancia es de poner de manifiesto que este gobierno ha incumplido claramente el calendario legislativo

el tono de su intervención al menos hoy no ha insultado a nadie y nos ha dejado una cosa muy clara

sí que fue prolijo en la actividad legislativa se aprobaron treinta y cuatro leyes

y trece quedaron en tramitación casi todas ellas por obstrucción de su grupo parlamentario el del partido nacionalista vasco esa es la realidad y esta iniciativa no viene a buscar meterle el dedo en el ojo al gobierno estamos simplemente describiendo una realidad y lo estamos haciendo además de modo constructivo estamos diciendo dense ustedes prisa

cuáles son las que tienen a su juicio se lo dejamos además a ustedes más importancia de cara a la ciudadanía porque sí es verdad señor arieta todas las leyes son importantes

a colectivos importantísimos de ciudadanos y otras que son meramente técnicas y que no tienen el mismo grado de afección lo único que les pedimos es que

para la acción de un gobierno de cara a conseguir el bienestar de los ciudadanos o aquellos temas que puedan resolver problemas

no parece que sea algo tan descabellado creo que además tendrían que agradecerlo porque es una muestra en cierto modo incluso de buena voluntad

que tienen entre otros la obligación de apoyar al gobierno buscando los consensos necesarios para apoyar las leyes claro hay que saber trabajárselos

va a hacer lo posible para que salga adelante ahora también le digo si no nos gusta porque nos parece muy mala

salvo que se cambie pero eso aquí y en todo parlamento que se precie

de algunas cosas pendientes que creo que además caen en todas en el ámbito de su competencia

la de fundaciones la de ordenación de los servicios jurídicos la de empleo público la municipal la de emergencias

ponga en marcha cosas que están paradas que no se convocan que no se reúnen en las ponencias ni en las comisiones

los trabajos y que la acción legislativa del gobierno tenga su reflejo en la cámara vasca pero no nos pida usted que hagamos solo lo que al gobierno le conviene

a decir amén amén a la que ustedes traigan nos guste o no nos guste y a la que ustedes no les tiene demasiado interés pues la meten en un cajón porque se acercan las elecciones

reivindicaciones se hacen para todos y aquí cada palo tiene que aguantar su vela y ustedes el suyo eskerrik asko pastor jauna eh bildutik

lo siento pero no comprende usted la diferencia entre la acción legislativa y legislar

supongo que tanto tiempo del partido popular haciendo como he dicho antes decretos leyes pasando la cámara por donde sea y todo este tipo cosas pues a usted le evita

cual es la formula pero bueno lo siento yo eso no se lo puedo resolver

que la proposición que han traído que no es una mala proposición que es una buena proposición

si ustedes con la proposición que han traído lo único que están diciendo es que no quieren

se trae para aprobar menos leyes y están ya adelantando que ponen un veto a una serie de leyes en base a unos supuestos plazos que no dan cuando ninguno de ustedes ha sido capaz de rebatirme ni uno solo de los datos que he dado he explicado en qué plazo se aprobaban las leyes en este parlamento y en qué plazo se pueden aprobar y que plazos quedan he dicho

otras más de un año y medio y otras más de dos años de plazo para aprobar

señor pastor tiene usted creo que algún dato distorsionado de los que ha dado ustedes en la legislatura anterior

presentaron seis proyectos de ley supongo que tendrían intención de aprobarlos aunque sea en la comisión permanente y digo esto porque presentaron un séptimo directamente

por lo tanto yo quiero creer que cuando se traen estas iniciativas y estamos hablando de la poca actitud del gobierno no sé si cuando dice actitud o aptitud si diferencia bien también porque en otro caso yo

aquí la cuestión señor pastor es ustedes

en la que se dice que se traigan más proyectos por otra parte nos están diciendo no

aunque de tiempo no esto es verdad porque la señora garrido ha dicho que no se van a aprobar literalmente

han firmado esta transacción y usted ha dicho que no va a haber tiempo para aprobar todas yo le he dado unos datos

estos datos en la mano y alguien que ha preguntado por ahí también no sé qué plazos están manejando pues mire los plazos que estoy manejando son los mismos que han manejado todo el mundo siempre aquí

esos son los únicos plazos que valen a día de hoy y con esos plazos da de sobra

si ustedes quieren justificar un veto a ciertas leyes en base a que no hay tiempo para aprobar no es verdad es falso por lo tanto

replantéese si están poniendo o no un veto digan si van a trabajar o no van a trabajar con absoluta lealtad y con el trabajo de todos nosotros los primeros mi grupo el primero

o no esa es la primera cuestión y la segunda cuestión no solo me reafirmo

sino que ha sido una iniciativa tremendamente perversa como se está viendo que ha procurado conseguir un veto en base a una serie de argumentos que no son reales y que ha venido en clave exclusivamente político partidista no en clave de poder aprobar más leyes como se está viendo descaradamente justo lo contrario

creo que la cuestión queda bastante clara en cuanto a la forma de entender la política señora garrido mire le voy a dar solo un pequeño dato la diferencia entre ustedes y nosotros usted el otro día en un programa de radio cuando estaba analizando

usted en vez de referirse a los ministerios en clave de ir a trabajar de responsabilidad política de poder implementar las políticas
con las que nos presentamos ante la ciudadanía amaitzen joan arieta araunabeña jauna usted sabe como

en todo momento como poltronas y lo repitió tantas veces como acostumbra usted cuando cree que algo molesta contar y repetirlo es decir continuamente

para nosotros no es intentar el ejecutivo es gobernar hacer un trabajo bien hecho y también las leyes

leyes que quieren consenso y leyes que quieren seguridad jurídica

yo cuando quiera este debate donde quiera y en el formato que quiera sobre la ley municipal y sobre la ley de vivienda cualquiera de las dos